el reino unido que juegan once contra once y que siempre gana alemania eta

ditugunean ba el parlamento es un lugar en el que los debates

o los grupos que sostienen al gobierno beraz aprobetxatuko

hoy es un día importante en esta cámara para el medio ambiente

práctica de conceptos como el desarrollo sostenible o la defensa de la biodiversidad probablemente ha sido casualidad pero son

en estas materias y en la actuación de nuestras instituciones al respecto

un viejo debate un arcaico plan de energía eólica bien muerto mejor enterrado hace más de doce años

unánime de este parlamento y casi unánime en las tres juntas generales esos son los antecedentes inmediatos

con una selección de emplazamientos exclusivamente económica es decir

previstos un plan fracasado sin consenso

concitó una fuerte contestación política y social si esto era cierto en dos mil dos o en dos mil nueve hoy lo es de forma

toda una serie de parques eólicos con un soporte de arqueología administrativa de espaldas a los ciudadanos y renunciando de antemano a cualquier consenso político el gobierno quiebra de hecho los consensos logrados en dos mil nueve para afrontar

pretende hacer de su incapacidad para sacar adelante un nuevo plan durante la última década que justifique que en dos mil veintiuno

los desatinos que se evitaron en dos mil nueve y en el caso concreto de los cuatro parques que se pretenden instalar en álava se tira por tierra además el consenso en torno al plan mugarri un plan aprobado en las juntas generales

o zepa paisajes sobresalientes o áreas de

han hecho un pleno al quince los cuatro parques los cuatro afectan de lleno a áreas de estas características nuestra posición

lo es en la enmienda que hemos planteado lo es en la proposición no de ley que luego debatiremos y lo era en nuestro programa electoral de hecho

en las instituciones forales como gobierno o como oposición en esta cámara cuando hemos sido oposición y cuando como en dos mil nueve respaldábamos al gobierno

sí a un plan de energías renovables consensuado sostenible que respete aquellos territorios y valores que todos hemos acordado preservar y al servicio del interés

y no a un viejo plan territorial sectorial de energía eólica desfasado sin consenso al servicio de intereses ajenos al interés general

legar a las generaciones futuras en mejores condiciones que como lo recibimos nuestro programa electoral para el dos mil veinte desde marzo

plan de energías renovables todas las ubicaciones no desarrolladas del primer plan por ser manifiestamente insostenibles citábamos

entre sus lugares a preservar es decir si las energías renovables sí

renovables pero eso no significa carta blanca no significa en cualquier lugar de cualquier modo a cualquier precio

la energía eólica deja de ser renovable y sostenible para ser simplemente sucia la versión eólica del más viejo desarrollismo

alguna salvo a la rentabilidad industrializar las cumbres alterar irreversiblemente el paisaje afectar al hábitat de especies que

y que tienen la más alta protección de la normativa europea nacional y autonómica transformar espacios protegidos en centrales energéticas insostenibles son todas ellas actuaciones incompatibles con cualquier concepto de desarrollo sostenible el pnv

durante más de una década ahora han cambiado de posición o quizás de interés hay que preguntarse por qué las prisas

el plan de energías renovables por qué dinero público y participaciones públicas para impulsar esos parques eólicos y no

conceptos qué necesidad tiene iberdrola

a cambio de qué a beneficio de quién con qué compromisos futuros por qué una multinacional prestigiosa

acepta manchar su nombre y su logo implicándose en parques polémicos insostenibles de alto impacto ambiental algunos

por eso eran ubicaciones secundarias hay algo que no conocemos señores del gobierno señora consejera de desarrollo económico a la vieja usanza que no de medio ambiente ni de sostenibilidad demasiados intereses encontrados es difícil juntar los dos

u otros lugares de álava por ejemplo llama la atención que ustedes

que alejen de la toma de decisiones de euskadi

para que decida madrid y con participación pública vasca en la maniobra por eso porque lo que era malo en dos mil nueve

muchas preguntas y ninguna respuesta satisfactoria porque lo urgente es un nuevo plan de energías renovables y no un nuevo destrozó político social y ambiental quizás porque

no consentiría a esos parques porque queremos que las cosas se hagan bien desde el consenso y el respeto a principios que todos compartimos es por lo que planteamos nuestra enmienda habrá quien diga que para hacer una tortilla hay que romper huevos nosotros para las tortillas usamos los huevos de gallina

que son instalaciones industriales ubicaciones sostenibles no los lugares que quedaron a salvo de la industrialización y del desarrollismo

buenos días resulta sorprendente pero también llamativo que lo primero que diga sea que estoy plenamente de acuerdo con la intervención que ha hecho la representante del partido popular y la verdad es que es

y habría que conducir a ciertas reflexiones en la medida en que fuerzas políticas que han mantenido posiciones tan divergentes en relación con el desarrollo económico y también en lo que respecta a la conservación medioambiental pueden llegar a un punto en común en una cuestión como esta yo creo que la pandemia que vivimos nos hace olvidar

hace unos años una declaración de emergencia climática una crisis climática que ha sido producida por la

principalmente a la quema de combustibles fósiles los vehículos a gasolina o diesel la calefacción a gas de las viviendas o la generación energética a base de carbón o gas producen las mayores emisiones transicionar del viejo modelo de energías fósiles a un nuevo modelo basado en las energías renovables

y los expertos y expertas sin embargo dependiendo de cada región y dependiendo del partido político que ostenta el gobierno esta transición se hace

o se hace de otra euskadi y esto es una realidad lleva más de veinte años paralizado en el gas y los hidrocarburos y para prueba la posición del partido nacionalista vasco en relación con su insistencia en los pozos

a las deducciones al diesel así como sus menciones permanentes a la necesidad de disponer

con el gas extraído de argelia veinte años

básicamente porque a ciertos oligopolios energéticos no les interesaba perder negocio y se estaban lucrando con el petróleo y el gas sin embargo ahora vuelve

o se establece la fiebre de las renovables y como se observa que el acuerdo de paris y el pico del petróleo se acercan todas las petroleras incluida repsol se vuelvan en el mercado eléctrico y empiezan a pujar en las subastas eléctricas para obtener el máximo

renovable y este cambio en los mercados lo estamos viendo en la aceleración que han tomado los proyectos de energías renovables en euskadi hemos pasado de cero a cien en apenas un año y como fuerza política ecologista

nos alegra pero al mismo tiempo nos disgusta nos alegra obviamente porque entendemos que es el camino a seguir pero nos disgusta por el modelo de negocio

el modelo de generación de energía renovable que ustedes están fomentando en euskadi es terriblemente injusto es terriblemente injusto para el medio ambiente es terriblemente injusto

para las empresas es terriblemente injusto porque siguen perpetuando el oligopolio energético y es terriblemente injusto

a perpetuidad cuando podemos invertir masivamente en autoconsumo energético y que la luz nos salga casi gratis cuál es el modelo del pnv a falta de aprobar el pts de energías renovables un modelo

a empresas como iberdrola o grupo mondragón y que afianzan su monopolio en la generación de energía renovable

un modelo que ocupa cientos de hectáreas de suelo rural y zonas protegidas porque es mucho más barato que promover proyectos en cubiertas edificios públicos industriales un modelo que centraliza la generación energética en unas pocas empresas para crear una sociedad de unos pocos que generan electricidad y unos muchos

renovables ha dado el gobierno vasco un acelerón recientemente el megaproyecto solar de ekienea que ya se ha mencionado en armiñón cien hectáreas de extensión de suelo rural

solares una inversión de setenta millónes de euros la inversión se distribuye entre iberdrola setenta y cinco por ciento el eve y diputación foral alavesa veinte por ciento y krean grupo mondragón cinco por ciento el proyecto

industrial arasur lo mismo

una inversión de veinticuatro millónes participada por el eve y veintidós empresas en las que

fundación vital luego estarían los parques eólicos los cuatro parques eólicos que también se ha mencionado exactamente lo mismo el sesenta por ciento de participación

en total doscientos cincuenta megavatios de potencia eólica y ciento veinticuatro megavatios de potencia solar instalada todas en araba y en todas

aparecen como socio preferente y nos preocupa nos preocupa mucho que

actualmente un plan para que el gobierno vasco facilite proyectos a determinadas empresas

molestos trámites de autorización y evaluación de impacto ambiental a estas empresas un plan para que estos proyectos salgan adelante con la ayuda del gobierno vasco y todo ello para ayudar a empresas como iberdrola que en dos mil veinte reconoció beneficios record

millónes de euros y se nos viene a la mente una serie de preguntas

energéticas por qué no están abiertos estos convenios a otras empresas cooperativas energéticas o ciudadanos

para ustedes pero también terriblemente injusto para el medio ambiente entre las dos megaplantas solares ya han ocupado ciento cincuenta y cinco hectáreas de suelo rural suelo cien por ciento alavés en la que la falta de zonas urbanizadas

y con bajo coste en este punto acaso sería interesante saber

los terrenos porque todo esto también pinta o va camino de considerarse otro pelotazo urbanístico

un modelo basado en proyectos otorgados a dedo a empresas afines mediante convenios sin abrirlos a otras empresas

protegidos por todos estos motivos

que consideramos que es mucho más acertada que la enmienda presentada por los partidos que sostienen o los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno

después en el último punto de esta sesión que vamos a volver a hablar básicamente de lo mismo seguramente llegaremos a un mismo posicionamiento común con las fuerzas de la oposición

la necesidad de revisar estos planteamientos del gobierno vasco en relación con las energías renovables eskerrik asko eskerrik asko soto jauna

tras escuchar atentamente las intervenciones que se han venido realizando

así como las respuestas que dio en su momento la señora consejera sinceramente creo que es mucho más lo que nos une en esta cuestión que lo que nos separa

preciso recordar de nuevo que nos encontramos en un momento histórico las decisiones que hemos tomado y las que nos quedan por tomar en los próximos meses marcarán un cambio de fase

la insostenibilidad de un sistema basado en el hiperconsumo y la ceguera para ver para no ver la brecha que estábamos abriendo

en los últimos cincuenta setenta años pero los socialistas no hemos estado parados ante los retos que se nos presentaban

el motor necesario para llevar a buen puerto los compromisos internacionales para lograr la neutralidad climática decía ramón rubial primer lehendakari de la democracia

que la verdadera revolución es la que se hace día a día en el boletín oficial del estado de los dichos a los hechos

los socialistas hemos plasmado nuestro compromiso con la descarbonización y la neutralidad climática en el plan nacional integrado de energía y clima dos mil veintiuno dos mil treinta es decir los socialistas hemos trazado la hoja de ruta que nos marcará el camino a transitar hasta conseguir llegar a los objetivos marcados para el dos mil cincuenta

nadie puede dudar de nuestra firme apuesta por liderar la transición energética de este país la descarbonización va a requerir dar pasos firmes en dos sectores clave la descarbonización de la economía y la descarbonización de la movilidad ambos aspectos van íntimamente ligados

y esta a su vez requiere de avanzar en el desarrollo de energías limpias por ello es más necesario que nunca acelerar todas aquellas políticas de impulso de energías renovables es necesario disponer a la mayor brevedad de un plan territorial sectorial de energías renovables de euskadi un plan que debe basarse en la eficiencia energética en la implantación de energías renovables en el autoconsumo y en la generación distribuida la implantación de energías renovables en euskadi debe contemplar el desarrollo no solo de las eólicas sino de la solar

la biomasa el hidrógeno y todas aquellas energías renovables que nos permitan como país mejorar considerablemente nuestro mix energético un plan

sino que ha de consensuarse a su vez con las diputaciones forales para permitir también el despliegue del autoconsumo y generación distribuida a menor escala

cooperativas solares que permiten el empoderamiento ciudadano y la democratización de la energía

debemos desarrollar de manera conjunta el plan territorial sectorial de energías renovables que permita mejorar la competitividad de nuestras empresas ya que la energía

y por ello debemos fomentar el despliegue de energías renovables como apuesta clara de apoyo a la misma tampoco podemos olvidar lo ha dicho aquí el señor otero

como ustedes bien saben en torno al noventa por ciento de la energía que consumimos

en contraste nuestra producción propia de energías renovables es muy baja con una producción que supone en torno al siete por ciento del total pero todos estos planes debemos hacerlos de manera consensuada y bajo un nuevo modelo de crecimiento

y bajo un desarrollo sostenible por todo ello es necesario nuevas instalaciones de renovables en el país

luchar contra el cambio climático y proteger nuestra biodiversidad por ello desde nuestro punto de vista debemos estudiar las formas de hacer confluir todas estas políticas

y la de biodiversidad para asegurar el desarrollo de las mismas minimizando los impactos y buscando medidas correctoras y compensatorias que nos permitan avanzar hacia el escenario obligado

total en nuestra economía para el año dos mil cincuenta hasta aquí como he dicho

de que todo o al menos buenas partes de los grupos que componen esta cámara estarán de acuerdo con lo expuesto

es verdad que los objetivos que nos hemos marcado son ambiciosos y que el ritmo que llevamos nos obliga a tener que acelerar para no quedarnos atrás

la ciudadanía cada vez más concienciada ante el reto que se nos plantea como humanidad no entendería que nos entretuviesemos una vez más por eso mismo no tenemos tiempo que perder

de forma rigurosa y solvente son garantes de la salvaguarda de los espacios de especial protección todo proyecto está condicionado a la existencia de una declaración de impacto positiva

cuenta con las medidas compensatorias necesarias para garantizar que se está haciendo adecuadamente no es momento de volver a posturas pasadas de paralización de proyectos sino que es el momento de búsqueda de soluciones sostenibles equilibradas que nos permitan avanzar como país porque de no hacerlo no solo estamos condicionados no estamos condicionando nuestro futuro energético

sino que estaremos condicionando nuestra propia economía y la competitividad de nuestras empresas es hora de una política con altura de miras en la búsqueda de soluciones energéticas y sostenibles gestionar con criterios y conocimiento los proyectos de energía renovable ahora nos posicionarán en el cumplimiento de los objetivos climáticos del futuro insisto

la salvaguarda de nuestros espacios naturales de especial protección euskadi está en una situación de emergencia climática es el momento de tomar decisiones mirar hacia adelante
con responsabilidad pero también con determinación nada más muchas gracias eskerrik asko alonso jauna

esaten duen bezala y ya sé que no hace falta porque se echa las flores usted solo señor otero

dice usted que gana todos los debates me parece perfecto les falta el de ganar las voluntades para sentarse ahí en lugar de donde se sientan

pero en cualquier caso y a pesar de que como digo creo que usted no lo necesita yo quiero poner en valor no solo todo aquello en lo que estamos

la disposición que usted ha manifestado estos días para poder llegar a un acuerdo un acuerdo al que podríamos haber llegado porque coincidíamos en un noventa por ciento del texto que ustedes planteaban y nosotros planteábamos pero bueno las rayas rojas sus rayas rojas y nuestras rayas rojas

por la misma zona no sé si protegida o no protegida pero se encontraban exactamente

plantean ustedes en el primer punto de su moción que el parlamento en el contexto de emergencia climática inste al gobierno a que impulse una expansión renovable responsable perdón ordenada y firme de las energías renovables yo a esto le contestó que el gobierno vasco siempre ha trabajado y así lo va a seguir haciendo

con el paisaje con el patrimonio cultural con el medio socioeconómico con la seguridad y salud y por supuesto con los valores ambientales en este sentido en colaboración entre los propios departamentos del gobierno vasco se realizan análisis exhaustivos sobre los instrumentos de planificación gestión y legislativos relacionados tanto con el ámbito de las energías renovables

de modo que la implantación de esta sea compatible con los mismos esto no les vamos a poner aquí

que se han establecido en todos los ámbitos geográficos de nuestro entorno es decir aquí en el estado y a nivel europeo

atendiendo al potencial recurso disponible en cada ámbito geográfico y a los condicionantes territoriales

valorando al mismo tiempo el beneficio que la implantación de este tipo de instalaciones

que ahí hay otra oportunidad a la reactivación del sector de empresas auxiliares y a la focalización de proyectos en las zonas rurales

energías renovables acción por el clima y creación de empleo de calidad y riqueza del país en el segundo punto nos dicen el parlamento insta al gobierno a que presente el primer borrador del plan territorial sectorial de energías renovables cumpliendo el plazo establecido en la disposición adicional cuarta de la ley

bien por situarnos aprobamos la ley de sostenibilidad energética a finales de febrero de dos mil diecinueve dentro del plazo de dos meses que la propia ley establecía el gobierno se pone a trabajar en la documentación necesaria para llevar adelante

en julio si no me equivoco del pasado año la consejera sacó digamos a

las aportaciones que se pudiese hacer para dar respuesta a lo que la ley exige

el documento de avance y el documento inicial estratégico y si no me equivoco

respecto a lo que planteaba la ley si no me equivoco llevamos dos semanas de retraso ahora hace falta poner en marcha el documento

y ahí también se ha venido diseñando en estos últimos meses también es donde la ciudadanía puede tomar parte donde se dará un proceso de participación ciudadana y donde entre todos y todas

huecos a ese consenso al que se apela o intentar acercar las posturas que es lo que plantean ustedes en su tercer punto

insta al gobierno a que presente los medios y mecanismos para conseguir el mayor consenso político social e institucional posible en el proceso de aprobación definitiva

yo doy por hecho que bajo esas premisas de consenso se está trabajando pero no solo para el proceso de aprobación de este

que en el ámbito de la energía y el cambio climático se están llevando a cabo en este sentido también

si no se hiciese de esta manera sería imposible coordinar todas las diferentes acciones que se están llevando a cabo

cuyos objetivos tienen que estar coordinados alineados y ser lo más realistas posible

ningún problema quiero decir lo mismo que usted creo que estaba de acuerdo en un tanto por ciento muy importante de la enmienda que nosotros habíamos presentado pues hasta aquí nosotros

en el punto cuarto cuando dice que mientras se aprueba el pan se paralicen todas las tramitaciones de centrales eólicas que se han puesto en marcha ha anunciado con el fin de conseguir una

en que la situación ideal sería la de tener el pts de energías renovables

estamos en marcha y no quiero echar la mirada más atrás porque ese debate ya lo hemos tenido en innumerables ocasiones en esta cámara sin embargo precisamente por lo mismo que dicen ustedes porque estamos en situación de emergencia climática creo que es

euskadi de aumentar la aportación energías renovables especialmente de la eólica a la generación eléctrica para alcanzar los objetivos marcados

que aprobamos hace dos años y así avanzar

descarbonizado yo creo que si el objetivo realmente es esto en este momento

de una manera suave la paralización de los proyectos de aprovechamiento de energías renovables mientras no esté el pts aprobado

primero no va a seguir repitiendo que este gobierno no ha hecho nada en dos años segundo

no verdad y entonces vamos a perder dos años vamos a llegar tarde a todos los compromisos que hemos asumido

su tendencia natural es la de más más más pero luego hay que llegar vamos a ser todos leales con lo que décimos y con lo que planteamos

es que son zonas protegidas bien perfectamente precisamente por eso

o sin él cualquier proyecto de energía renovable tendrá que acomodarse a aquellos lugares

y sea posible compatibilizar la instalación con la preservación de la biodiversidad y de los valores naturales paisajísticos y culturales de la zona

de energías renovables no significa en absoluto la desprotección del territorio frente a los parques eólicos

los sucesivos controles ambientales territoriales y urbanísticos al margen de los propiamente energéticos a los que está sometida la autorización de un parque eólico

con la ordenación del territorio y con la preservación de los valores ambientales de la zona por cierto señor soto

su gobierno se aguanta así

que solo se dará tras superar la correspondiente evaluación y declaración de impacto ambiental y ello al margen de la licencia urbanística de obra resto de permisos licencias autorizaciones que pudieran ser necesarias en el caso concreto en tales trámites el promotor deberá acreditar que el parque eólico que pretende implantar tiene cabida en el marco de la ordenación territorial

y que es compatible con los niveles de protección que ofrece la normativa ambiental y el resto de instrumentos de ordenación y gestión ambiental

eólico debe limitarse a la protección de la que estamos dotados

bueno primera réplica que luego habrá más un par de apuntes le dejo señor alonso

en madrid puede ser que no hayan estado parados aquí no me queda tan claro que hay hoja de ruta que hay que liderar que tiene que ser consensuada decía pues eso a eso es a lo que venimos a que sea consensuada porque ahora mismo los planes

que perder sobre esto vamos a seguir hablando lo de tiempo que perder o el tiempo que ganar porque

durante ese tiempo verdad yo hay una cosa que le digo

error que creo que ha tenido que decía que está garantizada la compatibilidad con los valores ambientales porque los informes de impacto ambiental los hacen los técnicos del gobierno vasco no es verdad el informe de la evaluación de impacto ambiental el informe de evaluación de impacto ambiental si se hubiera leído

consultora privada así que no meta al gobierno a los técnicos del gobierno vasco

señalar y es usted está dispuesto a que

no se va a ver demasiado pero lo hago porque las referencia es el miteco el miteco

controlan desde la vicepresidencia cuarta ha hecho

para el despliegue de las renovables que está claro que viene y va a ser masivo

para la eólica en esa zonificación para la eólica ha decidido digamos que

el cincuenta por ciento del territorio y por lo tanto no está recomendado poner eólicas su ministerio de transición ecológica evidentemente

pero le invito a que entre para que vea cómo tanto

en base a ese no hay nada de tiempo que perder usted está dispuesto a saltarse vamos a decir el criterio que su propia vicepresidencia ha establecido con respecto a la zonificación ambiental yo con que me conteste esto me doy por satisfecho eta

compatible o no compatible con la preservación nik uste dut zuek ere konturatu zaretela ez dela bateragarria o sea

lo deja muy claro y ustedes en la propia enmienda que han hecho

apelan al artículo cuarenta y seis de la ley de patrimonio y biodiversidad y es curioso porque

también también lo hacen porque después de calificar

el propio informe de evaluación ambiental califica que los impactos potenciales previstos en el parque después de analizar todo

que el global de los impactos analizados del presente proyecto después de la aplicación de medidas preventivas correctoras y compensatorias se valora globalmente como moderado severo y como se sabe que incluso aplicando medidas correctoras el impacto sobre la zona de especial de conservación va a ser moderado severo es decir

patrimonio cultural paisajístico y para el estado global de la conservación de la zona especial de protección se apela en la introducción a las medidas compensatorias a ese artículo cuarenta y seis de la ley de patrimonio natural estatal en la que se dice que las medidas compensatorias están destinadas a compensar los impactos que no se pueden evitar

o corregir mediante medidas preventivas o correctoras es decir

en las que se han planteado los proyectos va a haber impactos sobre la red natura dos mil y que se van a hacer unas medidas compensatorias para ayudar por otra parte a aquello que sobre

vamos a fastidiar impactar llámese como se quiera están asumiendo muchas cosas muy gruesas cuando están

evidentemente existe pero la prisa no lo justifica todo podemos seguir hablando

todos un poquito nosotros esa disposición a movernos la tenemos pero desde luego ahora con la prisa de hacer algo que no se ha hecho durante los últimos doce años algo que estaba acordado en este parlamento como los pts y tal ahora no sé hasta qué punto

del destrozo que puede suponer esto y como luego habrá otro punto

gracias venimos del consenso general del dos mil nueve todos estábamos por desechar aquel viejo plan

señor soto ustedes no estaban en esta cámara en dos mil nueve la novedad

el descarado cambio de intereses del pnv ahora al servicio de la mera rentabilidad a costa del medio ambiente por cierto cuántos edificios públicos disponen hoy de energía solar porque han pasado dos décadas desde la estrategia del cambio climático

se propuso se aprobó y no han hecho nada eso es perder el tiempo ustedes están haciendo lo contrario desarrollo

sin plan de renovables descarbonizar a costa del territorio es lo contrario a la sostenibilidad lo de generar la energía donde se consume es una absurdez genera en álava y lo atribuyen a los consumos de bizkaia o gipuzkoa hay que producir en sestao toda la energía renovable

pues es absurdo quienes no han hecho nada en doce años no pueden decir que no hay que paralizar proyectos la consejera nos decía que ahora cada turbina puede producir cuatro veces

turbinas de las antiguas pues por qué no adaptar los parques viejos

o se incrementa la potencia de las instalaciones existentes no la apuesta es multiplicar la incidencia en los lugares más frágiles y mejor preservados

de nuestro territorio el planteamiento es estrictamente de productividad y beneficios no de sostenibilidad y

renovables sí pero no en cualquier lugar

o a cualquier precio ni el carro delante de los bueyes ni los parques del plan y el señor grajales lo ha dicho la clave está en lo que usted ha dicho puede que dentro de dos años no sea posible la instalación de estos parques

puede que los planes de dentro de dos años no lo permitan hacer política a hechos consumados también no es una buena forma de actuar y no es voy a decir puede llegar a ser incluso

la transición el gas lleva veinte años en marcha y veinte años de retraso llevamos en euskadi en relación

del gas no entendemos que se afirme que ahora tenemos que acelerar los tiempos y que en un plazo de un año tenemos que comernos básicamente

en espacios protegidos porque en veinte años

ningún plan ningún proyecto que ataje esta situación no entendemos cómo es posible que

se planteen megaplantas solares utilizando zonas protegidas y

de los edificios públicos de euskadi existen miles y miles de metros cuadrados en las cubiertas de los

y de los ayuntamientos miles de metros cuadrados en las viviendas de vpo

creemos que hacia ahí habría que ir no entendemos la razón por la que se promocionan estos proyectos que sí creemos que debiesen de

que como se decía en dos semanas estarán

por qué no haber esperado a entonces por qué este acelerón tan apresurado de los tiempos teniendo en cuenta que los plazos tan cortos creemos que el vector

que lo rige todo tiene que ver con el nicho de mercado esta cuestión para el oligopolio eléctrico y que básicamente ustedes en este caso atienden a los designios y a los deseos de determinadas empresas energéticas de este país por cierto

donde más puertas giratorias existen por algo será y por lo general siempre en relación con los partidos en este caso que sostienen al gobierno

de atajar la solución mediante la oportunidad que ofrece obtener energía local

sin depender de terceros pero desde una perspectiva de soberanía energética de reducción de costes energéticos de nuestras empresas haciéndolas más competitivas rebajando la factura

pero esto en correlación con no atentar contra la biodiversidad y contra los espacios protegidos de nuestro país que creo que es

que por acelerar los tiempos tenemos que en fin atentar contra espacios protegidos

lo que achacamos a los partidos que sostienen al gobierno o al gobierno mismo es que no ha cumplido los plazos los tiempos los objetivos que se persiguen en fin me parece

un tanto cínico creemos que se tiene que ir hacia un modelo

que no centralice la generación energética en un pequeño oligopolio eléctrico que deje de ayudar a empresas afines

sintomático que prácticamente todos los proyectos que pone en marcha el gobierno vasco de cierta entidad pues en ellos haya una cofinanciación

que no ayudan en nada a empresas o cooperativas energéticas que también existen en este país y que podrían participar de estos proyectos creemos que en este caso no se está siendo

ambicioso y que se está aprovechando básicamente el cumplimiento de los acuerdos de parís y de la tramitación de leyes tanto a nivel estatal como

autonómico para que esto sirva de nicho de negocio y ya está o en su defecto que los cumplimientos de estos objetivos vengan

rendimientos económicos para determinadas empresas en esa idealizada vía del acompañamiento público privado para el sostenimiento de los objetivos que debiesen realmente de ir dirigidos al interés general y no al particular creemos que lo público privado siempre tiene que estar sujeto al mantenimiento del interés general y en este caso creemos
que no se cumple eskerrik asko eskerrik asko soto jauna

vamos a tener ocasión de volver a hablar de esta cuestión y yo creo que realmente las posiciones

los de unos y otros simplemente algunas reflexiones así

yo creo que tenemos que ser lo suficientemente sensatos de hacer una planificación de la necesidad real energética de este país no solamente digamos que buscando alternativas más o menos en una pequeña o mediana escala sino que teniendo en cuenta la necesidad energética

una de las partes que mayor peso de esa industria es de alto consumo energético no entonces esto va a requerir

planificación seria pero teniendo en cuenta estas cuestiones

por otro lado también tendremos que debatir en algún momento me imagino sobre la necesidad de corredores energéticos que nos permitan también de alguna forma tener ese borde de la piscina al que agarrarnos en los momentos en los que necesitemos energía en esta transición

se me ha interpelado directamente y pues oye yo intento en la medida de lo posible

es un mapa que es orientativo y que lo que va definiendo son diferentes zonas y el criterio que esas zonas tienen según la vista del ministerio luego en el momento en que se quiera desarrollar

que son los que tengan que ver no es una palabra digamos vinculante y exigente sino que es una cuestión orientativa que luego te va derivando a la necesidad de un estudio más o menos profundo en la materia

dentro de dos puntos eskerrik asko alonso jauna

sí damos por supuesto desde el grupo parlamentario euzko abertzaleak nacionalistas vascos es que toda actividad humana

y también tenemos claro que el desarrollo sostenible debe perseguir definir proyectos viables compatibilizando aspectos económicos sociales y ambientales de esas actividades humanas tres pilares que deben de tenerse en cuenta

dicho fin euskal herria bildu de verdad

que el que os entienda que os compre cuando no se hace porque no se hace cando se hace porque se hace todo os pilla mal

habréis tenido vuestros argumentos a veces otras veces menos

y a la vez apoyamos a los que quieren que no se toque una brizna de hierba en el monte y a la vez a los de aquí y a la vez a los de allá pues igual como precisamente estamos en una emergencia climática como precisamente tenemos que cumplir con unos objetivos

y decir hasta aquí sí hasta aquí no esto sí esto no porque si no yo de todas sus intervenciones no todas las de euskal herria bildu sino de todas las intervenciones de la oposición hoy aquí

de sí sí energías renovables sí energías renovables sí pero not in my back yard energías renovables sí lo mismo que el gas

fuera fuera fuera aquí no que nos molesta entonces

vamos a ver si de alguna manera somos capaces de acercar posturas y de no tomar todo desde una postura digamos maximalista yo creo que ustedes están acostumbrados

en la cúpula en algún sitio tome una decisión

y van todos al alimón puede ser una cosa y la contraria en dos semanas eh pero en eso

que tienen una capacidad estupenda miren yo pertenezco al último reducto

pero es que además estoy orgulloso de ello creo que tenemos un sistema en el que los propios equilibrios internos ya no estoy hablando del partido sino del país funcionan y funcionan bien entonces

a través de una empresa pública plantea luego estarán los ayuntamientos las diputaciones para decir esto sí esto no y eso no crea ningún trauma pero ustedes ya

ya tienen la imagen verdad en un piso muy alto de algún lugar ya se han juntado los de las puertas giratorias con los del partido para repartírselo para no sé qué

pero no nos pongan en la situación de que es álava la débil no no álava tiene sus ayuntamientos

álava tiene su diputación que hará lo que tenga que hacer y a partir de ahí ya veremos y señora larrea no diga cosas que yo no he dicho yo he dicho que con pts o sin pts la protección de los montes la protección de las zec de las zepa de la red natura dos mil es la misma

en cuevas no porque seguro que tocan algo o en el salón de nuestra casa pero desgraciadamente insisto insisto las energías renovables

inciden inciden podríamos tener todos en casa verdad en la terraza alguna cuestión algún pequeño molino que nos hiciese pero desgraciadamente esto todavía no funciona entonces yo les ruego a todos les pediría vamos a andar juntos vamos a caminar juntos

queremos energías renovables pero que nos las traigan de por ahí que aquí no vamos a cumplir con ninguno de los parámetros que nos hemos marcado

adelante adelante eso es su gobierno nos tiene a tope a tope a una con ustedes

que yo ya le adelanto sin hablar con el señor esteban que tienen nuestros votos para hacerlo eskerrik asko grajales jauna

el parlamento vasco insta al gobierno vasco conjuntamente con las diputaciones forales a elaborar en el plazo de seis meses un plan de gestión

betetzen ari hori da hemen gertatzen zaiguna es decir en euskadi al no aprobar el plan de gestión

la ley por eso sorprende también que cuando hemos presentado esta iniciativa hoy el pnv

en la que nos propone dos cosas por una parte en lugar de insistir o de aceptar que se trabaje ese plan lo que se nos pide o lo que se enmienda es

para crear una mesa de trabajo una mesa de trabajo que solamente parece querer retrasar el trabajo de la aprobación de este plan más allá de eso en esta enmienda nos incluyen otra cuestión que es la siguiente quieren saltarse la ley quieren saltarse la necesidad la obligación de aprobar este plan acogiéndose al artículo dieciséis punto uno de la directiva

para no proteger a la especie como son el entender que la especie supone una amenaza a la ganadería extensiva y al interés general

europea el único artículo al que se quieren acoger es precisamente a la excepción

su excepción pero claro si nos fijamos además en este artículo dieciséis claro indica que la excepcionalidad se podrá admitir cuando no exista ninguna otra solución satisfactoria y cuando ello además no suponga perjudicar a las poblaciones de la especie

se debería enviar un informe a la comisión europea a europa en el que y europa debería dictaminar si la excepción está

y creen ustedes de verdad que europa se lo iba a justificar que lo iba a admitir que entenderían en europa que media docena de lobos sea una amenaza

de la directiva o creen que lo aceptaría cuando ni siquiera se ha elaborado un plan de gestión no existe no se ha propuesto ninguna solución

para matar al lobo y que causa un perjuicio además esta excepcionalidad es obvio porque

en euskadi se creen de verdad que en europa iban a aceptar esta excepcionalidad

nosotros y desde luego sobre todo ustedes no tienen que olvidar que existe vida más allá de este parlamento y de la mayoría absoluta de este parlamento existe europa también

y hay que tenerlo siempre en cuenta qué pasa con el lobo por qué por qué esta manía al lobo

oso gaiztoa da eta hain gaiztoa da akabatu egin behar dela ese es el único plan de gestión que parece apoyar este gobierno vasco que es el de aniquilar el de matar a los lobos

mostrando por cierto la misma sensibilidad ambiental que puedan tener trump o bolsonaro en sus respectivos lugares

vamos a hablar un poquito un poquito aunque sea de los cazadores esta clase privilegiada que en plena pandemia ha podido saltarse el confinamiento

a que el gobierno vasco y las diputaciones bueno se lo han pedido porque parece ser que más allá de la pandemia por covid hemos tenido pandemia por jabalíes también

pero claro por qué tenemos sobrepoblación de jabalíes por ejemplo no será que hemos

que el único depredador que tienen no lo estamos protegiendo si no hay lobo

y no tenemos para olvidar tampoco cuando la diputación foral de álava

único lobo que había en álava un lobo pero matarlo por cierto otro dato hablando de cazadores

saben no sé si lo saben cuántos accidentes y muertos han originado los accidentes de caza en dos mil veinte solo en dos mil veinte

por accidentes de caza y seiscientos personas heridas cuántos muertos heridos hay por personas digamos por

cero en todo caso es verdad que cuando se defiende que hay que matar al lobo

en nombre de los intereses de los ganaderos vascos la ganadería extensiva la oveja está en peligro

en el fondo todo el problema del lobo se reduce a esta cuestión y es verdad es verdad que la existencia del lobo es un problema para los ganaderos

plantear un dilema o tener que elegir entre ganadería

la cuestión es hacer que los ganaderos que la ganadería pueda coexistir con el lobo

fin que tendríamos que perseguir desde las instituciones y entonces escuchemos a los ganaderos qué nos están diciendo los ganaderos que necesitan de nosotros bueno pues desde luego lo primero que nos dicen es que los precios de sus productos están por debajo

entonces si este es uno de sus más graves problemas uno de sus principales problemas por qué no hablamos más bien de los tratados

pnv psoe y pp por cierto votan en europa a favor

tienen que competir con otros países con salarios más bajos y con ningún control además ambiental

mayor problema para los ganaderos estos bajos precios y en todo caso si hablamos también del lobo y hablamos de la coexistencia del lobo

que es necesario profesionalizar la ganadería extensiva nos dicen que se necesitan más pastores

para que el ganado esté seguro por las noches nos dicen que hacen falta ayudas económicas por ataques del lobo sean ayudas por cada cabeza de ganado muerta ayudas por abortos causados por estrés o ayudas para servicios veterinarios en caso de heridas

alimentación de los mastines nos dicen que necesitan ayudas para la instalación de corrales

ganado por las noches se ha aprobado alguna de estas iniciativas es decir cuando en la enmienda el pnv está pensando

cómo se le va a explicar a la comisión europea que necesitamos esta excepcionalidad cuando resulta que no existe ninguna porque no existe ninguna solución satisfactoria cuando

del lobo es más resulta que teniendo en cuenta que aquí es uno de los pocos lugares donde se puede ver al lobo

y parques donde el lobo puede ser una fuente de ingresos turísticos porque nos permite poder verlo en realidad si nos acogemos a esta enmienda yo no sé si el lobo es enemigo

retrasar el plan de gestión

hasta cuándo lo vamos a retrasar en dos mil siete teníamos al partido socialista pidiendo este plan de gestión del lobo no perdamos más tiempo

ese plan con todos los agentes los ganaderos y todas las asociaciones ambientalistas también y sin olvidar además que estamos obligados estamos obligados por la ley a elaborar este plan de gestión la mesa de trabajo no es la solución puede haber una mesa de trabajo pero que trabajen mientras se está redactando también este plan de gestión

no de aniquilación controlar las poblaciones mediante batidas es la última tiene que ser la última alternativa y solo cuando todas las demás no han sido suficientes por todo ello por todo esto que digo

esta pnl esta iniciativa para iniciar y aprobar lo antes posible

en coordinación con las diputaciones forales y mediante foros de participación en la que se incluyan a todas las partes interesadas incluidas también

a desautorizar cualquier medida de control de poblaciones como las batidas de caza que

al estar el lobo incluido como especie protegida tanto en el catálogo vasco como en el catálogo español legalmente estamos obligados no retrasemos más

gracias señora presidenta buenos días señoras señores parlamentarios no siempre el lobo implica miedo también representa un buen turrón y no da ningún miedo dicho esto una fuerza silenciosa recorre europa una fuerza que no encuentra oposición la fuerza verde el ecologismo

un ecologismo que se preocupa de ahogar a nuestro sector primario haciéndolo inviable

al uso de fitosanitarios y estableciendo normativa sin parangón en el resto del mundo bien con la ganadería marcando a nuestros ganaderos unas exigencias altísimas que hacen que el resultado de su trabajo tenga un coste muy alto

que aceptan productos que no cumplen estas normativas productos que por tanto son más competitivos y que ahogan sin remedio al sector primario

autoimpuesta por europa una europa que beneficia los del norte y nos deja a nosotros a los pies de los caballos nos encontramos con la protección del lobo la protección a diestro y siniestro una protección que se limita a eso a proteger lo cual está muy bien pero dejan al ganadero derrotado

de animales que no siempre se cobran obligándoles a vivir de las subvenciones hasta que entiendan que el fin que le tienen reservado es otro el del abandono de la producción estimados ganaderos todos los partidos en esta cámara salvo vox apoya eso de lo que seguro que han oído mucho hablar la agenda dos mil treinta una agenda

de carne imponernos un modo de vida el suyo a costa de renunciar a todo lo nuestro

y es que no se puede es que se puede proteger al lobo sí pero no con diecisiete planes autonómicos diferentes

o en catalán solo desde el punto de vista nacional con una estrategia de control común se puede abordar este problema y es que

desde vox lo tenemos muy claro nuestros ganaderos primero respeto hacia su trabajo respeto

y sobre todo dejarles ganar dinero para subsistir que eso es lo único que piden eskerrik asko martínez andrea euskal sozialistak

presidenta señorías en la política las ideas las iniciativas

filosofía albergan contenidos pero también albergan dimensión y yo espero que el debate que hagamos en esta cámara el que estamos haciendo

tenga la dimensión de esta cámara la dimensión de lo que representa el lobo en la política vasca y por lo tanto qué es lo que debemos podemos

desde aquí es cierto que desde esta cámara podemos pronunciarnos políticamente

supongo que no se trata tanto de hacer un debate de adhesión a la iniciativa política que se hace desde el gobierno de españa

sino a la dimensión que debemos de darle aquí en lo que el lobo representa aquí en los pasos que ya se han dado aquí y en los que debiéramos dar

y como se explica en la iniciativa de elkarrekin podemos hasta el cuatro de febrero de este año el lobo se encontraba incluido en el catálogo español de especies amenazadas

solamente a las poblaciones de lobo al sur del río duero a partir de esta fecha esta catalogación aumenta y entonces en ese proyecto

las cosas empiezan a cambiar desde marzo del año dos mil veinte también en el país vasco como también ha citado la señora gorrotxategi en el catálogo vasco de especies amenazadas de fauna y flora silvestre y marina se incluye el lobo en la categoría de interés especial

por decisión propia en el país vasco una determinada protección aunque esa protección pueda tener diferencias con otras protecciones como la que en el fondo se está discutiendo

las dos disposiciones legales referidas exigen abordar la situación del lobo en euskadi

la culminación del plan de gestión del lobo tal como lo propone la iniciativa y también la enmienda presentada por los grupos nacionalistas vascos y socialistas vascos es cierto como ha planteado la señora gorrotxategi que existe un matiz en relación a si presentarlo directamente o si como se está intentando abordar en todos los lugares este asunto que parece que desata muchas pasiones y muchos encuentros y desencuentros

porque no se trata de vencer en este asunto sino que se trata de convencer

se trata de intentar poner a las partes afectadas de acuerdo y eso exige un poco más de debate un poco más de diálogo la iniciativa sola del gobierno elaborando un plan de gestión y presentándolo a esta cámara el debate desde luego apunta a que será complejo

cuántos lobos tenemos en euskadi cuántos tenemos en euskadi dónde están

sobre esto debiéramos debatir y debiéramos debatir porque el lobo está considerado como un animal insustituible

y en los hábitats que ocupa interviene ante la propagación de enfermedades en las especies

y ayuda a equilibrar el número de individuos las superpoblaciones como la que se ha citado aquí hoy

hasta ahora andaban por los alrededores pero ya están en vitoria han bajado a hacer compras

de todos los animales que están dentro de la fauna bueno pues el lobo también juega un papel de equilibrio y además yo creo que esta parte digamos que más de ciencia

poner de acuerdo sin embargo la pregunta de más complejidad ante las bondades del lobo

como un elemento de reclamo turístico y de generación económica extraordinaria

para que digan que sí que en su pueblo hay mucho turismo en relación al lobo pero bueno más allá de estas bondades que se plantean

cuántos ejemplares se necesitan por cada zona geográfica

porque efectivamente si en el país vasco no sabemos si tenemos uno o dos o como mucho entre cuatro y seis no sabemos si tenemos manada o no que parece que no no sabemos si va y viene

de los lindes del país vasco hombre pensar que la bondad

a determinadas enfermedades pensar que el equilibrio

de la fauna por ejemplo en relación a la masificación de especies como

uno o ninguno entre cuatro y seis

esto representa un elemento de regulación

poco lógico y por lo tanto como se plantea en

se evalúe el riesgo que significa tener un lobo o alguno más de uno sus ventajas

en relación a la naturaleza etcétera esto es lo que se plantea en la enmienda en relación con la directiva europea

venía un poco a cómo afear este asunto diciendo oiga ustedes creen que en la unión europea esto

esta directiva la aplica de una forma muy garantista para la conservación de la naturaleza luego no hay problema que nosotros no incluyamos en este asunto fiel reflejo del artículo dieciséis punto uno en esta enmienda es un reflejo de decir

cuál es la aportación del lobo en la comunidad autónoma vasca y si es necesario o no su asentamiento si es necesario o no su especial protección si necesitamos que haya lobos o no en el país vasco teniendo en cuenta que esto no es castilla y león

donde efectivamente el lobo puede cumplir todas esas funciones que se están planteando porque

como para trabajar por la protección y además

como por ejemplo el sector ganadero para protegerse en relación

por tanto es evidente que el debate es un debate que tiene interés que merece la pena

que merece la pena buscar la participación y que merece la pena verla desde todos los ángulos no solamente desde un solo ángulo

porque es evidente que la estrategia para la conservación y para la gestión del lobo en españa está ya en marcha

que además ahora se trata de actualizar hay una estrategia que quiere establecer

poblaciones viables de lobos pero repito poblaciones viables de lobos si es que eso también se plantea en el análisis de la situación por parte

en cuanto a su protección se trata por lo tanto de asegurar junto a esa recuperación su conservación

promoviendo la recuperación natural donde sea ecológica y socialmente razonable asegurando su expansión hacia territorios donde la conflictividad con los usos ganaderos

y en esta tarea se ha previsto instalar implantar sistemas de protección de ganado eficaces de manera generalizada en zonas de mayor conflictividad

de indemnización y compensación de depredaciones de lobos sobre ganado a través de sistemas de peritación homogéneos y pagos ágiles y justos para las personas afectadas como puede apreciarse se está tratando de un debate integral

polarización entre sectores sociales contrapuestos y esto claro que exige tiempo y debate

la biodiversidad es absolutamente necesario pero

y hay que intentar atenderlos y resolverlos desde luego que el debate es supercomplicado tratar de poner de acuerdo al lobo al potro a la vaca a la oveja al ecologista al cazador

en fin es muy complicado y encima a varios grupos políticos además de la izquierda

en fin estamos ante un debate pues que prácticamente es como una torre de babel muy complicado precisamente por eso nosotros queremos abrir el debate hacerlo con el mayor número de asociaciones

que aporten su punto de vista que podamos hacer consensos amplios y que en todo caso le demos a este debate

aquí y lo que debiera de representar en el futuro eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak suso jauna zurea da hitza

aquí está bueno yo me voy a centrar en la decisión de la comisión estatal del patrimonio natural y biodiversidad de miteco que aprobó

la inclusión en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial

del lobo ibérico esto se hizo como bien dice usted el cuatro de febrero no se puede ocultar que la

en principio por el voto en contra del país vasco madrid andalucía y murcia además de castilla y león asturias cantabria y galicia estas últimas cuatro

de los ejemplares actualmente del lobo además navarra y la comunidad valenciana renunciaron a votar

es cierto que por primera vez el ministerio lleva la propuesta de este tipo sin haber logrado un consenso especialmente en aquellas comunidades que albergan la mayor parte de los lobos en el estado

se abre el camino para la prohibición de su caza para el control y regulación de la especie

puedan ser gestionadas directamente con normas cinegéticas o contemplando esta posibilidad

el posicionamiento es idéntico al que se aprobó en el

de asturias cantabria castilla y león y galicia que son

de los lobos del estado actualmente la presencia del lobo en euskadi es puntual en ecología una población es un conjunto de individuos de una misma especie que habita en un área geográfica concreta

y que tienen un escaso intercambio genético con otras poblaciones de la misma especie desde esta perspectiva los lobos presentes en el país vasco en euskadi no forman una población en sí misma ya que el lobo es una especie que necesita grandes espacios vitales se puede afirmar

forman parte de la población de lobos de la cordillera cantábrica un lobo puede desde su manada cien kilómetros en un día puede ir y puede volver

en el último censo estatal que se llevó a cabo en todas las comunidades autónomas entre el año dos mil doce y dos mil catorce

localizándose casi todas ellas en el sector noroeste del estado

entre ocho y veinte miembros por tanto

al punto medio más bajo podemos decir que en el estado

en euskadi el máximo tamaño profesional reciente del lobo se alcanzó en el bienio dos mil siete dos mil ocho en el que se detectaron cuatro manadas

en la comunidad autónoma vasca llevado a cabo entre dos mil diecinueve y dos mil veinte

pero no así de manadas o grupos reproductores en este momento podemos destacar la presencia de animales solitarios que pueden moverse

espacio territorial no forman una manada propiamente dicha por lo menos

pero pueden aparecer en cualquier momento y además también pueden asentarse en manadas en un tiempo

es que un lobo aislado un lobo solitario puede generar

yo no voy a poner en duda la importancia que tiene el lobo en la cadena trófica efectivamente pero en esa cadena trófica su importancia está en la caza de animales silvestres lo que ocurre y aquí viene el problema es que normalmente

y en ese sentido genera daños importantes en euskadi

de ganadería extensiva son en principio y se lo digo por experiencia incompatibles para la convivencia

entre el lobo y la ganadería extensiva es conocer poco o nada el modelo de ganadería tradicional en euskadi la mayor parte de los

de este tipo de ganadería son rebaños de oveja latxa que se basa su gestión en el modelo denominado

pasan los inviernos en los valles y en el periodo estival

donde pastan libres y en extensivo una de las ventajas que tiene este modelo de actividad es conservar los extensos pastos

los paisajes de estos montes lo que constituye además un hábitat comunitario prioritario y son la base de la red natura dos mil normalmente este tipo de espacios se dan en álava y en bizkaia preferentemente

preferentemente en estos pastos es la oveja latxa la oveja latxa no es una oveja grupal

por tanto está mucho más expuesta a los ataques de lobo

ya que es más fácil atacarla al no exponerse a los perros

que vigilan el rebaño yo personalmente he visto cómo

extensiva la gran mayoría de ellas ha dejado los rebaños de ovino por los ataques del lobo

las mismas contestaciones por parte de los defensores de la protección del lobo que las administraciones públicas como usted dice establezcan ayudas para hacer frente a los daños producidos por la especie y yo me pregunto alguien trabaja

para su mejora genética de los animales para que su modelo de vida

la respuesta es no en esta situación es imposible mantener las explotaciones

y he dicho anteriormente que tenemos individuos aislados de lobo y a pesar de todo

han tramitado setecientos veintisiete expedientes

porque hay un plan de gestión que lo analiza permanentemente y entre dos mil cinco y dos mil diecinueve

que han sido heridas muertas o desaparecidas

ataques se han hecho en álava y el treinta por ciento en bizkaia actualmente como es

el área de medio ambiente del gobierno vasco aprobó en febrero del pasado año la inclusión del lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas con la categoría de interés especial

que podrían haber llevado a diferentes conclusiones todo ello con el voto mayoritario en contra del consejo asesor de la naturaleza

también es cierto que el departamento de medio ambiente llegó a la conclusión de que el lobo

que ver en euskadi la consideración de especie en peligro de extinción no

procede por tanto su inclusión en una categoría reservada para aquellas especies de supervivencia improbable si los factores causantes de su situación

si no son de interés especial merecedoras

en función de su valor científico ecológico cultural o por su singularidad todo ello nos lleva a proponer

que sea el gobierno vasco en trabajo conjunto con las diputaciones los que impulsen una mesa de trabajo con los agentes socioeconómicos interesados

para la elaboración del plan de gestión recogemos en parte lo que usted señala en su primera propuesta además efectivamente incluimos que se tengan en cuenta las medidas excepcionales que están

de hábitat si es incompatible con el mantenimiento de la ganadería tradicional y lo hacemos porque usted lo que propone en su segunda propuesta

las batidas de caza por tanto no estamos hablando que eso es el plan de gestión

la ecología lo que debe predominar y eso no contradice con controlar la biodiversidad eskerrik asko

la posición de mi grupo en relación con esta proposición no de ley y de las enmiendas presentadas proposición que no podemos separar del momento preciso en que nos encontramos y de las circunstancias que lo rodean porque todos somos conscientes evidentemente

de las especies avanza es más factible logran mejores resultados cuando se acompaña del consenso social y político especialmente cuando se trata de especies

de su importancia ecológica tienen un impacto en la vida de los bienes de las poblaciones de aquellos lugares donde habitan quiero preguntarles

si les han contado qué es lo que les sucede que se levantan antes de las cinco de la mañana

su rebaño y qué sucede cuando se lo encuentran atacado cuando se encuentran dispersado cuando encuentran algún

las cabezas de su rebaño es que estamos hablando de su modo de vida estamos hablando de la ganadería extensiva que es

en euskadi es que no podemos pensar hablar del lobo sin hablar de los ganaderos es que solo en su pnl solo hablan del lobo

es importante es importante porque no se puede recuperar una especie sin saber cuáles son las consecuencias dentro de lo que ya está asentado aquí y nosotros tenemos que defender esa parte que no está incluida en su pnl a los ganaderos

cargas y pérdidas para quienes conviven con ella el recorrido de la protección y su efectividad será

por ser claros es fundamental que los beneficios de la protección de las especies de la riqueza natural de una biodiversidad bien preservada y restaurada

que los lobos solo cazan corzos ciervos o

principal si solo fuera esto otro gallo cantaría

que pese a la supervivencia del lobo en el país vasco o donde sea no puede recaer sobre las cabezas de los ganaderos sus bienes o sus familias sabiendo además que cuando hablamos de ganadería extensiva como es nuestro caso la complejidad y las dificultades son

mayores y que también la ganadería extensiva el modo que la modela el modo en que modela el paisaje los hábitats la cultura que le rodea o las especies autóctonas que cría como la oveja latxa son parte importante

natural en territorios poblados y humanizados como el nuestro cualquier concepción de defensa del medio natural y de las especies debe

todavía debe tener en cuenta todavía más ese principio de implicación de la población

como en este caso los ganaderos pueden verse directamente afectados en sus medios de vida y en su patrimonio y por eso se debe actuar comenzando por ellos para que la continuidad de la ganadería extensiva no quede en entredicho

en particular y españa en general son buenos ejemplos de éxito en la gestión y recuperación de poblaciones de múltiples especies que hace pocas décadas parecían abocadas a la extinción

hay excepciones situaciones todavía precarias no faltan amenazas pero el balance general hoy nos permite hablar de unos espacios naturales y una biodiversidad

y con la preocupante situación de hace cuarenta o cincuenta años y es mérito de todos pero muy especialmente de la población rural de los agricultores

que contribuyen intensamente a preservar ese patrimonio natural pues bien a pesar de esa experiencia y de esas lecciones que pensábamos bien aprendidas

el gobierno sánchez iglesias ha optado en relación con el lobo por actuar exactamente en sentido contrario tomando decisiones sin consenso suficiente

ajustadas incluso al golpe de voto de calidad pretendiendo que con ello se refuerzan las opciones de futuro de la especie en el conjunto de españa seamos claros la controversia

en torno a la conservación es lo que más puede perjudicar el futuro de una especie todavía más el enfrentamiento entre las administraciones encargadas de su protección y gestión en particular de una especie como el lobo que siempre en todas partes genera un debate intenso cuando no

así lo hemos vivido también en el país vasco desde los años ochenta no se puede actuar peor que como hoy lo está haciendo el ministerio de transición ecológica

ni da amparo a los ganaderos ni respalda la gestión de las comunidades autónomas donde vive el lobo ni contribuye a cumplir los objetivos de la estrategia nacional de la especie

solivianta a los ganaderos a quienes desprecia y no ha tomado en absoluto en cuenta ignora la experiencia de aquellos que viven conviven los lobos olvida las lecciones de varias décadas en materia de conservación como antes decía y no contentos con ello dar lecciones yo creo que los socialistas no pueden dar lecciones en esta materia preparando este debate yo he encontrado algunas cosas curiosas

a la población local y a los gobiernos autonómicos no ha sido respaldada por ninguna administración de los lugares donde vive y próspera el lobo en españa ninguna

ni siquiera cataluña a donde han llegado en los últimos años los lobos desde italia que ya habitan buena parte de francia

por cierto esa es la forma de actuar de este gobierno

ha hecho bien en oponerse a una decisión que tal y como se ha adoptado en nada contribuye al objetivo que se propone y perjudica a todas las partes implicadas curioso es también ver qué ha sucedido con el lobo en los últimos años en españa

es donde menos daños se producen a la ganadería algo sabrán por tanto hacer bien las comunidades autónomas donde vive

galicia castilla y león la comunidad de madrid sin olvidar la gestión de la diputación foral de álava quiero resaltar esto durante los gobiernos del pp

también de la comunidad científica en relación al lobo quizás no sea casualidad que esas comunidades sean comunidades gobernadas por el partido popular

quizás no sea casualidad digo porque hay sitios donde hace cuarenta años había lobos no los hay gobiernos autonómicos socialistas que asistieron impasibles a la extinción del lobo y hoy dan lecciones a quienes han hecho posible su supervivencia

donde no hay constancia de la supervivencia del lobo desde el año dos mil trece

y décadas de gobiernos socialistas en euskadi en los últimos años el ararteko

han determinado una situación que tiene que ver poco con el resto de españa pero en la que por la pandemia o lo que sea

los más olvidados son una vez más los ganaderos

qué queremos nosotros en el país vasco queremos las experiencias de galicia de castilla y león de madrid queremos

de aquellos lugares en los que el lobo convive con ganado y se ha convertido en un recurso económico de primer orden por muy distintas

hablamos de una ganadería que forma parte de nuestra esencia misma y cuyas cualidades están siendo por fin defendidas desde europa no debemos impulsar explotaciones intensivas con animales estabulados en las que la producción prima sobre la calidad del producto y el bienestar de los animales

y distribuidoras pero que generan gran cantidad de perjuicios socioeconómicos y ecológicos

eso es lo que queremos creemos que no sin embargo la ganadería extensiva lleva siglos cuidando de nuestro paisaje nuestros montes limpiándolos de maleza mientras respeta nuestros ecosistemas

si no fuera por su presencia aun así cada día hay más distancia entre la vida rural y la vida de las ciudades y muchas personas toman partido

a nuestro entender esto no es adecuado desde un punto de vista urbanita y romántico pensamos que la comida llega

pero en las explotaciones de ganadería extensiva se levantan y se acuestan trabajando es una dedicación absoluta y aunque la mayoría piense que la relación que tienen estas personas que se dedican a la ganadería extensiva con los animales es meramente productiva se equivocan

en estas ganaderías son únicos se sabe quién ha sido la madre el padre si han nacido solos o en partos múltiples se sabe si alguna falta cuál es el que falta

y cuando se ve a estos animales sufrir quien se dedica a su cuidado sufre

con poco o ningún cuidado del bienestar animal que nada tienen que ver con la ganadería extensiva de la que estamos hablando quienes se dedican a la ganadería son personas que aman el territorio los animales

de su trabajo su modo de vida este es el modelo que defendemos es un modelo sostenible e imprescindible para el cuidado de montes y pastos para la vertebración del desarrollo rural

es la garantía de la calidad de los productos que comemos si cuando abordamos cuestiones como la de hoy

esta realidad si no actuamos con responsabilidad y tomamos medidas

estaremos alejándonos de un equilibrio sostenible que a nuestro modo de ver es imprescindible tengámoslo en cuenta

que haya que establecer una mesa de trabajo para ver en qué condiciones está el lobo cuántos lobos hay cuáles son los intereses en juego que participe todo el mundo en realidad eso es un principio también que también nosotras

admitimos lo que pasa que esa mesa de trabajo no tiene que ser

desarrolle este plan de gestión del lobo que lleva quince años desde que se pidió aquí desde que se quiso instar aquí por primera vez a que se creara lleva años y años incumpliéndose la ley porque la ley vasca nos exige que tengamos un plan de gestión es decir

una mesa de trabajo sí pero que se haga también un plan de gestión es ciertamente contradictorio que se hable como excusa para la no necesidad de este plan de gestión que haya pocos lobos

bueno y entonces por qué tanto empeño a través de las enmiendas en incluir la excepcionalidad por el

y además también se admitía que pudiera haber más lobos también en el futuro es decir una cosa no quita la otra hay poquitos lobos bueno los que sean

a redactar un plan de gestión del lobo también se decía claro es que es muy complejo esto es muy difícil hay que poner de acuerdo a muchísimas partes claro y

entonces es que si no fuera complejo para qué servimos

de regular las cosas sencillas acaso no es complicado también poner de acuerdo por ejemplo a los empresarios y los trabajadores

acaso regular sobre los derechos laborales nos obliga a elegir entre unos y otros no se trata de poner en acuerdo intereses que son contrapuestos y eso es la democracia reconocer que existe pluralidad de intereses y que todos ellos deben ser armonizados para vivir

va del plan de gestión de los lobos que no existe aun cuando debiera de existir hace muchísimos años y claro que hemos hablado con los ganaderos de hecho yo creo que en la defensa

ha quedado bastante claro es curioso como yo no sé si a veces creen que

como si no hubiéramos conocido un ganadero o un baserritarra en nuestra vida yo no sé si creen que de dónde venimos de marte

creen que vivimos cuando nos hablan de que no somos capaces de comprender los intereses del empresariado o de los baserritarras acaso creen que en nuestras familias no hay empresarios baserritarras y de todo no venimos de ningún planeta extraordinario de aquí de esta sociedad y claro que hemos hablado con los ganaderos de hecho hemos hablado tanto con los ganaderos que hemos recogido sus reivindicaciones y las hemos expresado

de conciliar los intereses del lobo de la protección del lobo y de los ganaderos y por lo que veo y somos la única fuerza política

somos la única fuerza política que está intentando insistir en la necesidad de conciliar los intereses de protección del lobo y también de los ganaderos

tengo que decir yo esperaba por su tradición

les pareciera mal esta iniciativa me sorprende más la postura tanto del partido socialista como de bildu del partido socialista porque va en contra lo que está defendiendo su propio partido a nivel estatal no estaría mal que de vez en cuando

a su socio de gobierno no estaría mal y me sorprende también la actitud de bildu y esta es un poquito como usted ecologismo de segunda es decir un partido que se declare ecologista y que no defienda que
un plan de gestión del lobo pues no les deja en muy buen lugar eskerrik asko gorrotxategi andrea mistoa

hace ya demasiado tiempo que los partidos políticos se han entregado a la bandera ecologista de la izquierda una bandera que enarbolan queriendo meter en ella a todos los demás

y creo que no porque existe una posición muy habitual por parte de su partido que tiene que ver con la criminalización del cazador como ha hecho usted hoy aquí la caza vista como una actividad furtiva por definición pero nada más lejos

los cazadores que lo sepan ustedes son los que más se preocupan por el medio ambiente los que mejor saben cómo están los montes los campos si hay plagas

no he visto a ningún ecologista en ese momento por allí también se lo digo los cazadores son una solución para nuestro campo para controlar el jabalí para saber cómo está la situación

lo saben ellos son y así lo han demostrado siempre una ayuda un elemento sobre el que apoyarnos y que nos sirve para abordar con mayor rigor

el decoro y el respeto que se merecen gracias eskerrik asko martínez andrea euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

con frecuencia dos cosas que se hacen en mi opinión con bastante desatino

una cosa muy habitual en todos los partidos políticos hay que marcar la diferencia y como hay que marcar la diferencia pues a veces perdemos la perspectiva de lo que estamos discutiendo porque hay que marcar la diferencia

suele ser la de una vez que hay que marcar la diferencia es no escuchamos a los demás porque ya venimos guionizados y no escuchamos a los demás

en la pluralidad política que puede haber en un parlamento por eso hay cosas que a veces tienen mucho valor y que no pasa nada

en un asunto tan espinoso como este que lo es

social que la tiene alguien plantea que tiene que haber equilibrio que tiene que haber proporcionalidad que tiene que haber diálogo

este asunto lo diga quien lo diga es importante esto ha sido las últimas palabras de la intervención de la señora etxebarria y me parece importante porque aquí en esta cámara salvo por sus últimas palabras señora gorrotxategi que probablemente son

efecto de lo que acabo de decir de que a veces no se escucha no he oído en ninguna intervención de ningún grupo político decir no al lobo

o decir no a la ganadería es decir que

parece que todos pensamos que necesitamos encontrar el equilibrio entre la defensa de la naturaleza y la defensa de la economía y efectivamente por eso nadie dice no a una cosa y nadie dice no es evidente que en política es mucho más fácil predicar que dar trigo y por supuesto que cuando por ejemplo decidimos no a las energías fósiles que lo décimos todos cuando planteamos pasar a las energías renovables ya la cosa es muy complicada

sí a defender la naturaleza cuando ya tenemos que dar pasos para ver cómo la defendemos ya la cosa es más complicada

y algunos dicen yo quiero ser el defensor del cazador yo quiero ser el defensor del ganadero yo quiero ser el defensor del lobo pero de manera exclusiva y eso es lo que impide seguir avanzando y ahí es donde está la virtud política

hoy aquí el grupo nacionalistas vascos y socialistas vascos decir que este es un debate que necesita por las contradicciones que genera

al montón al mogollón o sea lo más importante de aquí es hacer una crítica

pero el debate aquí es un debate

mucho más delicado mucho más complicado y por eso nosotros décimos hay que coger a todas las partes hay que coger

a los ambientalistas a los ganaderos a la política a las instituciones a los partidos

si queremos conservar la naturaleza y si entendemos que el lobo como otras especies que también están en amenaza

pues al igual que pasa con la energía para que a las personas no se nos vaya de la mano el control climático o por lo menos participación en el clima o participación en la defensa de la naturaleza para que el futuro no sea un caos medioambiental

claro que tenemos que poner de acuerdo a los sectores enfrentados o más o menos de acuerdo

y eso requiere tiempo eso requiere que hagamos una participación que culminemos el plan de gestión y que por supuesto veamos que en esa proporcionalidad y en esa complejidad que tiene el debate

estudiadas porque efectivamente si una especie animal en el país vasco nos produce un beneficio notable

es insignificante y lo único que nos produce es depredación y daño económico también habrá que valorarlo no lo estoy juzgando pero lo estoy situando en el debate claro quien cree que solo es ecologista él

a la humanidad es él efectivamente aparenta marcar posición y no necesita escuchar a nadie eskerrik asko

nuestra posición sí queremos un plan de gestión por supuesto y queremos la participación de todos los grupos socioeconómicos incluidos los ecologistas

hemos tenido planes de gestión no los que marca la ley seguramente

administraciones competentes sobre el lobo desde el año noventa aproximadamente y se lo puedo asegurar porque parte de ellos fueron de mi responsabilidad por tanto plan de gestión sí pero

solo existe un elemento que nos separa y es la compatibilidad de la ganadería tradicional con el lobo yo cuando

en euskadi no estoy pensando en que no existan esporádicamente algunos lobos solitarios en nuestros montes

imposible de aguantar porque el lobo no está en peligro de extinción en el estado tampoco en europa se dice que hay unos quince mil de ellos unos tres mil en el estado

ahora se están extendiendo algunos más en francia pero realmente los

y rumania en euskadi la presencia del lobo es puntual

igual la situación cambia de forma fundamental porque puede ser que sea imposible

por eso me pregunto debemos entender que el lobo tiene consustancialmente un derecho volver a todos aquellos territorios en los que estuvo presente alguna vez en su historia

estaba hasta su aparición en este derecho natural y preeminente

este es el derecho natural y preeminente sobre otros intereses generales o funciones públicas del territorio

acaso no se regula desde la ordenación del territorio el adecuado equilibrio entre distintos usos e intereses generales entrando a regular los que se dan en

y lo privado sería posible limitar y actuar la presencia del lobo en ciertas comarcas pretendemos que sean las tensiones y conflictos con la presencia humana la que fije el límite de expansión del lobo

estudios de idoneidad de hábitat para albergar poblaciones estables de lobo

y yo seguramente de otra yo en cualquier caso le puedo decir cuál es mi experiencia en la gestión del lobo y en la gestión de este problema yo estuve ocho años en la diputación de álava y en aquellos momentos era responsable en materia de ganadería también de agricultura tuve

hicimos un amplio estudio para conocer la especie contando para ello con los mayores especialistas en la materia que todavía siguen trabajando en euskadi contábamos

con amplios conocimientos sobre el lobo establecimos ayudas para sufragar los seguros ganaderos y como eso no resultó efectivo porque los seguros dejaron de hacer las pólizas aplicamos ayudas directas cuando se sufrían ataques yo mismo

que nos regaló la diputación de león en aquellos momentos para poder

a quejas por parte de ciudadanos que decían que molestaban cuando se iba al monte el mastín además de gestionar su comida porque claro yo estaría aquí uno pues nos tocaría el lomo en este momento a esta altura comen mucho

ellos atienden solamente a lo que es el ganado pero también tuvimos problemas en conclusión

es imposible entre el ganadero y el lobo y la

en algunos momentos por supuesto y eso se lo digo yo

en algún momento tuvimos que aplicar esas medidas excepcionales

es que muchas explotaciones han desaparecido y esa es la parte más grave y con ello también esa pérdida de hábitats naturales en los pactos de montaña hace cuarenta años existieron unas jornadas sobre el agua

pero había un agricultor de aquí de vitoria y

preguntó al aldeano y al gorrión con perdigón y dijo y al gorrión por qué

al lobo protección y al ganadero qué eskerrik asko eskerrik asko

clara en este tema la responsabilidad de llegar tarde y mal

la legalidad está clara y lo sabemos falta el desarrollo de un marco de ese plan de gestión que dé seguridad a todos a la hora de actuar seguridad jurídica

para que la justicia o el ararteko no tengan que cuestionar las decisiones de la administración seguridad

para que puedan afrontar las inversiones necesarias para afrontar su día a día el dinero

o el coste a incorporar o las mejores prácticas en el pastoreo

tiene que salir de una negociación hoy carecemos de ese marco porque ustedes

de retraso y no parecen dispuestos a cambiar bueno porque ahora hacen como que quieren hacer y nos presentan una enmienda sin compromisos claros y sin plazos para acordar con agentes socioeconómicos no sé si la comunidad científica o los grupos ecologistas caben en esa descripción

o los engloba en partes interesadas repito sin los ganaderos contra los ganaderos en el perjuicio de los ganaderos cualquier actuación está abocada al fracaso por eso pensamos que no hay voluntad real de diálogo y acuerdo porque ni el grupo proponente

todas las cartas sobre la mesa o afrontar todos los aspectos de una realidad compleja y sentarse para llegar a acuerdos sabiendo

o el abandono de los ganaderos a su suerte el lobo

a aprobar y desarrollar un plan un marco de referencia que garantice tanto el cumplimiento de la legalidad como el futuro de la ganadería extensiva

aun y todo sabiendo y recorriendo la historia de lo que ha sucedido con un plan en este sentido les vamos a dar un voto de confianza a los señores del gobierno a los parlamentarios que sustentan al gobierno

queremos pensar que están dispuestos a rectificar por eso vamos a apoyar su enmienda a la totalidad pero creemos que traza el mejor camino con la respuesta al futuro

para su mantenimiento y del posible lobo me hace mucha gracia porque yo auguro y creo qué pasará con el oso

señora presidenta lehendakari vicelehendakari señorías buenos días a todos bien esta iniciativa quiere llamar la atención sobre una necesidad una necesidad ya identificada en el tiempo no recordemos que el veintiocho de septiembre del dos mil doce

pidieron la máxima protección a los montes de vitoria a través de la declaración de los montes de vitoria como parque natural ahí está la declaración histórica desde luego

ya venían hace tiempo o los movimientos hablando de esa necesidad pero en cualquier caso

para nuestra provincia para vitoria y su municipio

la postura contraria del gobierno vasco años después en dos mil catorce y el hecho de las consecuencias que puede acarrear no proteger la totalidad del espacio nos ha llevado a traer esta proposición no de ley

esta cámara ya que el gobierno vasco es el mayor o el principal responsable

la protección del espacio natural la protección además que requiere todo este espacio natural los montes de vitoria de lo que estamos hablando hemos dicho siempre

en relación con esta cuestión todo lo que esté en nuestra mano para proteger este entorno natural de lo que son amenazas medioambientales

o de otro tipo la seña de identidad de vitoria de vitoria porque vitoria no solamente es una ciudad vitoria es un gran municipio es una política medioambiental ambiciosa moderna y decidida y no se puede echar por tierra el trabajo de tantos años o ponerlo probablemente en riesgo y ahora pues hay otras cuestiones pero la insistencia

que puede llevar a explotar gas puede ser

importante atrás en una referencia ecológica y ambientalista de esta ciudad de este municipio de vitoria gasteiz además

green capital es un trabajo de las administraciones por supuesto pero de todos los vitorianos

del medio ambiente lo que quiere decir ser la capital del mundo del medio ambiente y queremos seguir dando pasos en ese sentido los vitorianos y sus

tenemos una responsabilidad y tenemos además que dar ejemplo eso es

que exigen responsabilidad ya se ha trabajado en el pasado también por esta declaración que nosotros pedimos en la iniciativa de parque natural también lo han hecho desde el gobierno vasco y queremos desde luego que se retome ese trabajo

reduzca a la protección como ocurre en la actualidad a esa protección parcial parcialísima

y de lo que tenemos que hablar es de las cualidades de un espacio del espacio de los montes de vitoria entorno natural de ese espacio natural del que estamos hablando se pretende que se protejan las más de once mil o doce mil hectáreas los informes hablan

no solo las que se regulan que se protejan no solo las que se regulan en la zona de especial conservación

el gobierno vasco y algunas otras instituciones que resulta decididamente insuficiente sino la totalidad que es lo que queremos la totalidad del espacio natural montes de vitoria

nos molesta el gas en los montes de vitoria y en el municipio de vitoria gasteiz por las características que hemos hablado el gas estorba a la capitalidad europea del medio ambiente en este caso y es un elemento esencial también para poner eso en referencia la declaración de un espacio singular y que está reconocido por todos como la necesidad de que sea un parque natural un espacio de especial protección por eso nos merece nos parece adecuado

en dos mil diez cuando el gobierno vasco el doce de febrero firmó la consejera de medio ambiente en aquel momento pilar unzalu a la que veo sentada

un recuerdo de inmenso afecto firmó una orden una orden

de dos mil diez de la consejera de medio ambiente planificación territorial agricultura y pesca por la que se inicia

de elaboración y aprobación del plan de ordenación de los recursos naturales del área de los montes de vitoria eso de cara a la creación de ese parque natural a partir de ahí se dieron muchos pasos por parte del departamento de la consejera de medio ambiente y en ese sentido

las bases para la ordenación el uso y la gestión del área de los montes de vitoria

y era muy claro lo que decía ese informe en el año dos mil cinco para hacer un poco de historia el centro de estudios ambientales

de declaración de montes de vitoria como parque natural en dos mil nueve

del departamento de medio ambiente de la diputación foral de álava realiza una propuesta de delimitación para la declaración de parque natural que excede el ámbito municipal de vitoria gasteiz afecta a otros muchos municipios finalmente el departamento de medio ambiente planificación territorial agricultura y pesca del gobierno vasco sobre la propuesta aproximada de delimitación anterior publicó la orden por la que se inicia el procedimiento para todo ello paso previo desde luego del parque natural en dicha orden señala que el área de los montes de vitoria decía y eso es el elemento fundamental que sustenta esta declaración o que

es una de las zonas de mayor singularidad e interés ambiental de araba de álava y presenta un gran potencial natural con buen estado de conservación cumpliéndose así con varios de los criterios recogidos en el artículo diez de la ley de conservación de la naturaleza que le hace merecedor de su inclusión en la red de espacios naturales protegidos es el elemento esencial y ya se reconoce

esa necesidad previa desde luego a esa declaración de parque natural en su caso de la categoría de espacio natural protegido

de los recursos naturales para el conjunto de esa zona que planifique la conservación de los mismos

de espacios afectados es decir una serie de elementos muy importantes y de directrices para la gestión desde luego ese informe que encargó la consejera de medio ambiente establecía las bases para la ordenación el uso y la gestión de las áreas de los montes de vitoria como paso previo

el territorio que de acuerdo con los méritos ambientales que ahí estaban

el esfuerzo fundamental que entendió el gobierno vasco que había que hacer y otras instituciones es decir llegar a que los montes de vitoria formasen parte de la red de espacios naturales protegidos de la capv o sea fuesen un parque

se habló del porn se habló del instrumento de planificación

en relación con la determinación del ámbito territorial del estado de conservación

extensión de los límites territoriales una serie de cuestiones esenciales para dar los pasos

está claro también que se hablaba de cuál era el ámbito la delimitación del área de los montes de vitoria lo tenía lo definió perfectamente la diputación foral de álava es decir yo no tengo la capacidad del señor otero o del señor casanova o del señor betoño en sacar aquí carteles o sea que no lo voy a hacer es muy posible que lo haga el señor

ahí está ahí está la delimitación esa delimitación se ajusta desde luego a la contemplada en la propuesta de la diputación foral de álava de dos mil nueve de delimitación para la declaración de parque natural los montes de vitoria el ámbito municipal

zonas o sea que está muy claro y está muy bien trabajado es decir y se ha trabajado muy bien

que pase que se siga trabajando y que se retome todo ese trabajo que se hizo por parte de la diputación por parte del gobierno vasco por parte de consultoras por parte del ayuntamiento de vitoria gasteiz y lo que nos ha dado la calificación

que elementos como el proyecto de los montes de vitoria del parque natural de los montes de vitoria han sido esenciales para que seamos la capital verde europea la green capital o sea que ha sido esencial también es uno de los grandes pasos

y con las capacidades que tenemos para todo eso o sea que

vitoria gasteiz fue green capital entre otras cosas por la gestión del proyecto

de los montes de vitoria y queremos ser dentro de veinticinco años de nuevo capital europea del medio ambiente lo queremos ser y tenemos que trabajar y esto es un elemento esencial para volver a ser

o de cuarenta años este es un elemento esencial y desde luego el espíritu de la orden de la consejera

en el gobierno vasco y eso ha sido un paso atrás y en eso es en lo que debemos tratar de corregir en favor del desarrollo natural

que presenta todas las características esenciales

vasca de espacios naturales es imprescindible como pasa con otros parques naturales como ha pasado y pasa y se entiende perfectamente con izki con valderejo y con otros espacios etcétera etcétera ustedes los conocen muy bien

necesarias para que eso siga pasando tenemos precedentes además en vitoria gasteiz como municipio verde los precedentes de la firma

de la agenda veintiuno de vitoria gasteiz en mil novecientos noventa y ocho el anillo verde vitoriano premiado por la onu en relación con la defensa de la política sostenible verde en las ciudades los avances

vitorianos y vitorianas en relación con la recogida de basuras la movilidad el aire el consumo de energía el tratamiento de residuos deben tener su continuidad en la declaración que

propone a esta cámara y esa declaración es la siguiente es que el parlamento vasco inste al gobierno vasco a iniciar

el trabajo ya está hecho en buena parte la tramitación del expediente de declaración de parque natural sobre la totalidad del

montes de vitoria al objeto de garantizar la protección medioambiental del mismo asegurando de esta forma el desarrollo natural de las entidades locales

compatibilidad con la actividad agrícola y ganadera que sus habitantes desarrollan que históricamente ha propiciado el mantenimiento y buen estado de conservación

esas características medioambientales con una actividad humana perfectamente sostenible y que hay que

y a consensuar con la institución foral y el ayuntamiento de vitoria gasteiz

y acciones de protección que se proyecten o pretendan llevar a cabo en los montes de vitoria de manera que sea compatible

medioambiental con el respeto a los usos y costumbres existentes en la gestión de dicha zona también como un elemento fundamental en este sentido pues hay alguna enmienda que

lo que nosotros podemos decir o que lo define mejor y bueno en ese sentido

tercer punto es que el parlamento vasco insta al gobierno vasco a la diputación foral de álava al ayuntamiento de vitoria gasteiz a suspender el otorgamiento de licencias

para actuaciones en el ámbito del futuro parque natural mientras se tramite su declaración estamos viendo que hay amenazas que hay amenazas en relación con la calificación de esa zona su sostenibilidad amenazas en el futuro de un espacio natural protegido de un parque natural y en ese sentido no queremos que esas amenazas

como también lo hemos hecho en otras instituciones tenemos que decir que vitoria es más que una ciudad vitoria es un gran municipio y si fue

entre otras cosas por el proyecto de los montes de vitoria con ese proyecto orientado al futuro

que ha presentado elkarrekin podemos dice prácticamente lo mismo centrar más en la figura del plan de ordenación de naturales o sea del porn y en ese sentido pues bueno en lo que es la declaración del parque natural o sea que en ese sentido no tenemos ningún problema

y en relación con la enmienda de eh bildu está claro que lo que hace es completar definir de una manera un tanto más

y en relación con la enmienda del partido nacionalista vasco y el partido socialista

no podría ponerme es decir su la enmienda de totalidad
es absolutamente contraria es decir eskerrik asko barrio jauna eskerrik asko es reduccionista así que

dicho antes los montes de bueno la tramitación de esta figura de protección ya se comenzó en vitoria gasteiz

con el fin y el objeto de conseguir un parque natural sin embargo veinte veinticinco años después todavía seguimos debatiendo el mismo tema

estaba gobernando y patxi lópez se hacía fotos con el casco de obra y a favor del fracking en el territorio alavés

del plan de ordenación de recursos naturales de los montes de vitoria como paso previo a su declaración de espacio natural protegido eso sí

ya sea parque natural que es lo que después se ha ido votando u otra dos años más tarde en el borrador del plan de ordenación

en ese momento era el momento de recoger las mejoras las alegaciones de las entidades locales de los sectores afectados asociaciones y ecologistas pero misteriosamente ahí acabó el procedimiento ni se terminó el proceso de información pública ni se aprobó el plan de ordenación y se declaró parque nacional y el borrador del plan se guardó en un cajón

no sacó el plan del cajón donde lo tenía guardado en su lugar creó una figura de protección mucho menor el nuevo sistema de protección que se puso en marcha en este momento tampoco tuvo en consideración el borrador del plan de ordenación

del plan de ordenación sí tenía un estudio y un diagnóstico de los recursos de la biodiversidad y de los valores naturales y establecía una serie de criterios y limitaciones

todo ello con el objeto principal de proteger y restaurar la biodiversidad del territorio en marzo del dos mil trece como nos ha recordado el señor barrio la viceconsejera de medio ambiente anunció en comisión parlamentaria la intención de reactivar la declaración de espacio natural protegido del área de los montes de vitoria

continuar con la tramitación del plan de ordenación y todavía a día de hoy es poco entendible por qué se paró el procedimiento y por qué no se concluyó la tramitación de dicho plan

procedimiento que pretende proteger la naturaleza ante ciertas actividades económicas es suspendido la razón lo que nos dice es que se prima el negocio frente al medio ambiente y en el pleno de hoy qué nos propone el gobierno dar carpetazo al plan de ordenación

este trámite aprovechando que hay mayoría absoluta y en su lugar propone una pequeña ampliación

es decir seguir sin proteger la mayor parte de los montes de vitoria quieren darle carpetazo a toda costa al plan porque lo que les interesa es favorecer sus negocios

pues estamos con la exploración y la explotación de los pozos de gas o el fracking dificultar

el tren de alta velocidad pues hay dos túneles proyectados que atraviesan los montes también hay proyectos urbanísticos proyectos de parques eólicos alta tensión

lo que queda claro es que hay muchas razones políticas para no continuar con el plan y con solo proteger el veinte por ciento de los montes de vitoria

este mismo año el veintisiete de enero del dos mil veintiuno el ayuntamiento de vitoria por medio de los grupos elkarrekin bildu y pp votó a favor de declarar los montes de vitoria como parque natural

un tema que sus socios de gobierno parece ser que tampoco se sienten cómodos

y que tanto en el ayuntamiento de vitoria como en las juntas de álava ya se han posicionado en contra de continuar extrayendo combustibles fósiles estos son

porque no nos olvidemos que al igual que estamos en una situación de emergencia sanitaria desde el dos mil diecinueve euskadi también está en situación de emergencia climática y que la mejor manera para proteger el clima del planeta es además de invertir

es cuidar nuestros ecosistemas y nuestras especies hoy

creemos y nos importa la biodiversidad pero esto no va a ser así está claro que hemos decidido apostar por los negocios y no por la tierra pero es que más allá que un negocio ustedes deberían entender que la pandemia actual

hay mayor riesgo de virus zoonótico y ahora proteger la biodiversidad se ha convertido también en un aspecto clave de la protección de la salud la directora de salud pública y medio ambiente de la organización mundial de la salud

alertó sobre los riesgos de la deforestación y la destrucción de hábitat

más directo entre especies salvajes y humanos provocando transmisiones de enfermedades infecciosas víricas no solo el covid

afirmó que el setenta por ciento de los últimos brotes epidémicos ha comenzado con la deforestación la organización mundial de la salud ha confirmado que el origen del virus proviene de un animal no quedando claro si se trata de un pangolín un visón un gato o un murciélago y es que en

de interés comunitario entre los que destacamos hayedos robledales y zonas de pasto entre las especies amenazadas se encuentran diferentes tipos de aves anfibios reptiles y

en los montes de vitoria tenemos nueve tipos de murciélago con estos datos no pretendemos causar alarma innecesaria

que en muchas ocasiones siempre vemos peligro como algo remoto

y son y son espacios donde se deben aplicar políticas de protección y conservación pero hay que salvar el amazonas y los montes de vitoria no hay que salvarlos hay que salvar el orangután de borneo y el lobo habita entre burgos y vitoria no démosle valor a lo nuestro tenemos un espacio natural con una

con múltiples especies animales y vegetales con nueve hábitats diferentes nos interesa proteger su biodiversidad

no es el amazonas pero es nuestro ecosistema y es nuestra biodiversidad

y es hora de proteger lo que es nuestro eskerrik asko angulo jauna eh bildu taldearen ordezkaria otero jauna zurea da hitza

me ha gustado su intervención señor barrio tenga un poco de cuidado porque claro se pone uno a intentar

otero luego se pone a leer el discurso y en vez de su álava clásico

en perfecto euskera así que cuidado que de las filas de atrás le vigilan señor barrio nik orain

llegó el comandante iba a decir pero bueno el gobierno de urkullu mandó parar

no le hizo nada de caso a esto en dos mil quince jada eremuaren zati txiki bat

izan duten kontzeju eta herri txikiei esker izan da creo que tenemos una deuda histórica con los concejos y con sus habitantes

que no se debe ni olvidar en el proceso de creación del espacio protegido ni se puede obviar por eso

tiene que ser dar un papel protagonista a los concejos tiene que ser respetar usos y costumbres compatibilizándolos con los valores ambientales a proteger estableciendo

y aprovechamientos esta tensión que existe pero que no debemos eludir debe ser cerrada satisfactoriamente en el proceso de protección de montes de vitoria

porque la necesidad existe eso sí la inquietud porque la provoca que provoca la posibilidad de creación de un nuevo parque natural

a este y anteriores gobiernos no sobre la conveniencia de proteger o no más espacios que es lo que parece que sorprendentemente está infiriendo el pnv

de algunos parques naturales que han terminado por provocar bastantes resistencias pero también quiero decir que esa tensión que no negamos

y que en buena parte pueden explicar mejor las reticencias a declarar montes de vitoria parque natural

porque la enmienda la habéis firmado también aunque la haya redactado el pnv gure ustez

a tener entre nosotros otro clásico del parlamentarismo vasco de la última

los montes de vitoria cuando me he puesto a recopilar información entre los expedientes

el ayuntamiento de vitoria gasteiz o este parlamento la verdad es que me he quedado realmente

que hemos sido capaces de generar con este debate así que lamento decirles que este parlamentario no cree que pueda decir nada que no haya sido ya dicho en semejante cantidad de debates así que voy a ser breve y voy a intentar hacer también un breve recorrido histórico me ha llamado la atención porque efectivamente

cada punto en su lugar es verdad que mi cronología difiere un poco

ambientales propone declarar el área de montes de vitoria como parque natural un año después

los concejos afectados manifiestan su oposición a la creación del parque natural

porque marca lo que ha venido siendo la constante resistencia de los diferentes concejos a lo que literalmente consideran una imposición no se puede olvidar que vitoria es mucho más que el entorno urbano consecuencia de su evolución histórica

cómo se iban vinculando a ella más de sesenta concejos unos consejos que como todos ustedes bien saben se regulan por una serie de normas forales

y este debate a lo largo de sus más de quince años de historia en buena medida ha versado sobre esto sobre el reconocimiento de la autonomía que estos concejos tienen para la gestión de sus recursos naturales unos concejos

manifestaban su preocupación sobre la posible pérdida de competencias a favor de un supuesto patronato que gestionaría dicho parque natural y en el que ellos pasarían a ser solo una parte más

y en aquella fecha los concejos advertían de que la gestión de la actividad ganadera del aprovechamiento de los pastos

se verían directamente afectados en caso de que se decidiese seguir por este camino los concejos veían y ven amenazados sus derechos y sus ingresos por este tipo de explotación de recursos

en dos mil catorce las conclusiones de la memoria técnica relativa

más oportuno y efectivo para la conservación de los valores sería insistir

tanto los destinados a la conservación de biodiversidad como a sus elementos y desistir de la declaración de una figura superpuesta adicional que cuenta con una fuerte oposición pública

a veces da la impresión de que nos volvemos a encontrar en el histórico enfrentamiento entre ciudad y concejos de su entorno como si para ciertas cuestiones álava no fuera capaz de salir

pero ojo esta no es una cuestión que vaya de la cerrazón de unos concejos rurales contra la protección de sus espacios naturales

esos mismos concejos en dos mil dieciséis la representación concejil solicitaba abrir una figura de protección y conservación alternativas y acordes con la realidad del municipio de vitoria

altos de vitoria para adaptarlo a las exigencias de un espacio red natura dos mil

en primer lugar para dar mayor peso a los valores de la biodiversidad la red natura dos mil focaliza mejor los elementos a proteger

pero también porque desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad

porque no excluye el desarrollo rural respetando las reivindicaciones históricas de los concejos es más vincula ese desarrollo rural con su contribución a la conservación de la biodiversidad

quisiera recordar que la financiación europea solamente contempla los espacios incluidos en la red natura dos mil porque y aquí pasaría ya a la segunda parte de mi intervención

se propuso con la finalidad de proteger bosques de interés comunitario también relevantes en relación al cambio climático por su función de almacenamiento de carbono no mezclemos debates

o no de crear un parque natural en los montes de vitoria porque si lo que se pretende es impedir posibles sondeos son otros los caminos que se tienen que seguir en primer lugar

del pleno dejó claro que no quería el pozo pero es que además el plan general de ordenación urbanística

punto si lo que pretendemos las diferentes instituciones vascas ya sea el ayuntamiento de vitoria gasteiz

ya sea este parlamento es garantizar que en esa tierra no se van a seguir explorando

no nos perdamos ni por los cerros de úbeda ni por los montes de vitoria para lograr ese objetivo los socialistas lo tenemos muy claro solo hay un camino y desde aquí invito a todos los grupos de esta cámara a que nos acompañen en él en breve

que actualmente se encuentra en tramitación en el congreso de los diputados es la aprobación de esa ley la que nos permitirá zanjar definitivamente debates sobre la explotación y exploración de hidrocarburos pero no solo en vitoria sino en toda araba en toda euskadi y en toda españa

descartando la figura de protección de parque natural para los montes de vitoria creemos

y los derechos y competencias de nuestros concejos rurales nada más muchas gracias eskerrik asko alonso jauna

eskerrik asko presidente andrea señor barrio más de treinta años que no confrontábamos en una

aquellos años que nos encontramos en juntas generales que jóvenes éramos eh pero bueno usted es más experimentado que yo en estas lides sin ninguna duda bueno vamos a hablar de los montes de vitoria

yo siempre he oído hablar de este parque natural o cuando se iba a hacer la cárcel o cuando iban a poner los molinos en treviño los molinos un parque eólico en estos momentos también es cierto que

solicitó esa declaración y además que la gestión fuera por parte del ayuntamiento de vitoria

bien ese plan primer plan de ordenación que se ha hablado el inicial

barrio incluía varios ayuntamientos además de vitoria concretamente alegría dulantzi arraia maeztu bernedo elburgo iruña de oca iruraiz gauna y el propio vitoria gasteiz dos tercios del parque estaban en vitoria y un tercio en el resto de los ayuntamientos algunos les puedo asegurar que

a visitarlo en estos periodos de confinamiento desde entonces han pasado once años pero han pasado muchas cosas a mi entender por lo menos

y la presentación de alegaciones por parte de las entidades y personas interesadas

con cuatro alternativas sin definir y tampoco sin límites concretos

no se realizaron ningún tipo de consultas con los ayuntamientos al menos del territorio y con los concejos

en julio de dos mil doce se enviaron al gobierno vasco sesenta y dos alegaciones de los treinta y nueve concejos afectados

ustedes tanto un grupo como otro que la declaración de parque natural se realice permitiendo la compatibilidad de la actividad agrícola y ganadera

sobre este aspecto en el año dos mil trece el gobierno vasco solicita a los concejos una representación gráfica de terrenos a excluir y su respuesta

del porn en todo su ámbito concejil incluidos los caminos rurales las divisas los aprovechamientos de suelo y vuelo

en definitiva una respuesta categórica y concluyente que si uno la dibuja

trasladan le he quitado esta hegemonía que tiene usted con los cuadros pero

que cualquier declaración de espacios naturales protegidos conlleva normas y limitaciones que complican las actividades agroganaderas el propio plan de ordenación en esta delimitación inicial

prohibía mejor dicho veinticuatro actividades en este espacio concreto además también los ayuntamientos los ayuntamientos la mayoría de ellos también dijeron trasladaron que no se incluyera

de sus municipios desde mi punto de vista la ampliación de la superficie a otros municipios como decía antes algunos de ellos ni contiguos con gasteiz no fueron

se buscaban espacios bien conservados que permitieran dar consistencia a la declaración de parque natural de acuerdo a entonces ya ley de conservación de la naturaleza vigente y para ello solo hay que recordar aquella entrevista del entonces reconocido profesional y director de biodiversidad del gobierno vasco germán alonso donde afirmaba textualmente

no cuenta con elementos de especial valor incluso afirmaba no son el serengueti que como saben es un emblemático parque nacional africano incluso

el grupo municipal del pnv criticó aquellas declaraciones más la forma que más por la forma que por el fondo porque dentro de la delimitación propuesta

existían elementos naturales que debían de ser protegidos y así sucedió precisamente con la declaración de zona de especial conservación de montes altos de vitoria que en el dos mil quince incluyó dos mil doscientos veintiocho hectáreas además de un área

unas cinco mil hectáreas por tanto que se encuentran protegidas en este espacio natural

de interés comunitario destacando los hayedos también es cierto como se ha dicho que en el entorno de estos montes hay dos especies incluidas en el catálogo vasco de especies amenazadas dos

de una fauna especialmente de anfibios como en este caso de cualquier espacio protegido

que deben permitir cumplir los objetivos de conservación y de mejora medioambiental en la zona catalogada

y no donde la intervención humana en el espacio ha modificado la vegetación potencial en las tierras de cultivo

discrepamos por tanto de la propuesta que presenta el partido popular ciudadanos cuando dice que tanto la zona de especial conservación de montes altos de vitoria

y de actividades de explotación de los recursos naturales creo que es textualmente otra cosa

y que no figuran precisamente en la ley de conservación de la naturaleza y no es porque la gran mayoría de juntas administrativas y municipios incluidos en el previsible parque natural hayan dicho que no

porque tal negativa en muchos de los casos se podría haber negociado

parte de las torturas pero es que este espacio nunca fue localizado como protegible en los

previos a la catalogación de espacios protegidos en la ley de conservación de la naturaleza porque los valores a proteger deben ser objetivables en este caso se bajó mucho el listón respecto a los estudios científicos de los años ochenta

hace no mucho tiempo doscientos cuarenta estaba bien

otra cosa es que la red natura dos mil abriese nuevas características para la conservación de hábitats concretos y ello animara proteger montes altos de vitoria

algunos de ellos pero ampliar como se intentó desde nuestro punto de vista era un despropósito que no buscaba proteger valores

intentar evitar determinadas potenciales actuaciones la protección de espacios es para eso para proteger valores naturales preexistentes

males evitables por la numerosa capacidad normativa porque para evitar males evitables se puede utilizar la amplia y numerosa capacidad normativa en manos de todas las instituciones de esta manera y si por ejemplo y ahora que está de actualidad se quieren evitar los edificios altos en el medio de durango no hacía falta más que modificar el plan de gestión

del parque natural de urkiola ni tan siquiera habría que tocar el plan general

se amplía al parque natural y se acabó con el problema en definitiva lo que se pretende por algunos grupos proponentes

como algunas de las enmiendas es pervertir la figura de protección para los fines y objetivos que se crea y utilizarlos para según dice evitar las amenazas medioambientales

si fuera así y entiendo que no sucede existen otras figuras normativas que pueden ser utilizadas para ello

las ha citado mi compañero del partido socialista por tanto los grupos

es un elemento de protección que también lo dicen los responsables en materia medioambiental

o mayor en algunos casos que los parques naturales es una figura distinta de cara a la calle pero es una figura que realmente tiene idéntica protección lo que hace falta es

estudiar la posibilidad de ampliar esa extensión actual para proteger esos elementos relevantes naturales la figura de conservación y protección de ese espacio que creo que es importante pero dentro de la delimitación que hemos hablado además de ello creo que después de once años

y tiene que ver con la primera propuesta de que se cierre una vez se hable con los concejos y ayuntamientos y también de las propias actuaciones realizadas en materia de protección se los recursos naturales y se trabaje en la ampliación de esa

muchas gracias señora presidenta y

la coincidencia desde luego en este sentido y en relación con la protección y el pedir que se declare parque natural al señor suso desde luego

treinta años o más que sí que debatíamos en la tribuna pero afortunadamente lo mejor usted y yo no vemos por la calle por los pueblos de álava que es donde nos encontramos

esas fiestas de los pueblos y en esos momentos importantes de nuestra provincia que desde luego pues ahí es donde nos tenemos que seguir viendo

aquí también además en debates pues así moderados y tranquilos

tratan de ser mire no sé ha hecho unas referencias reduccionistas en relación con lo que debe de ser o entendemos que sea la declaración

nuestra referencia es una referencia de mucha categoría es

ambientales de vitoria gasteiz nos llevó a este municipio a la capitalidad europea a la green capital europea

por su trabajo en relación con nuestras condiciones y nuestras capacidades por el hecho de ponerlas sobre la mesa por el hecho de instar y de hacer que las instituciones el ayuntamiento de vitoria la diputación foral de álava el gobierno vasco trabajasen en relación con esa declaración

ese es el mismo institución especializada que nos ha dicho y que nos ha convencido y que ha convencido

y que les convenció a muchos de ustedes también hace muchos años de la necesidad de hacer un parque natural en los montes

que está justificado en relación con los informes que se hicieron en relación con el tema faunístico con lo vegetal

la institución esencial para vitoria gasteiz para su municipio y en este caso también para una solidez y una solvencia en los estudios que se hicieron para

desde luego no todo estaría bien hecho en el enfoque principal del

en relación con algunas cuestiones y ya sabemos que a la hora de hacer y de abordar un

que lleve a la consecución de un parque hay que dar mucha confianza a los concejos pero todos sabemos lo que queríamos en relación con ese tema o lo que se quiere no solamente es dar confianza sino preservar y mantener la identidad de los concejos sus usos sus actividades tradicionales sus costumbres eso es lo que tiene que hacer también

porque vamos a tener y vamos a generar y vamos a ganar en valor con la declaración del parque natural y también esos concejos lo iban a hacer yo creo que es decir no sabía que en el gobierno vasco respetuosos con las alegaciones de los particulares en relación con las normas hay que ver muchas leyes y muchos decretos qué caso hacen ustedes a las alegaciones de los particulares cuando tienen

porque vamos a ganar todos y ustedes también porque van a tener más prestigio también en relación con la gestión institucional de parques de estas características

no habría parques naturales no habría parques naturales porque en todos los sitios hay concejos

que se ven afectadas no lo que ustedes tienen que hacer desde las instituciones que ustedes gobiernan todas es dar confianza dar confianza en este caso a los ciudadanos y dar confianza a la capitalidad de vitoria gasteiz en relación

un elemento esencial el señor alonso importante volumen de documentación que ve que hay y efectivamente porque es muy importante el objetivo que se trata de conseguir también ha hablado de las reticencias de los concejos bueno pues bien para ello hay que hacer un buen plan de ordenación de recursos naturales es una oportunidad además ese plan para despejar dudas para despejar dudas para mantener esas cuestiones que hemos hablado la actividad los usos las costumbres de esos sitios el hecho de que se responde además a las amenazas

y que ustedes de alguna manera la están gestionando es decir por qué se oponen por qué se oponen a que los montes de vitoria de verdad es decir el partido socialista probablemente por imposición del acuerdo de gobierno pero el partido

por qué se oponen a enriquecer la vida natural de vitoria gasteiz la vida natural de álava no lo entiendo eskerrik asko barrio jauna

por qué estamos todavía así estamos en medio de una crisis sanitaria climática de biodiversidad

han pasado cuarenta años y hay que adaptarse a los nuevos tiempos

las directivas europeas que nos dicen que hay que proteger los ecosistemas y nosotros seguimos aquí

en la que todavía los miembros de este parlamento en la que todavía viven los miembros de este parlamento y eso nos preocupa nos preocupa pues siguen viendo el ecosistema y nuestro territorio

el mundo cambia ante un escenario de colapso por la biodiversidad debido al cambio climático y nuestras políticas no pueden seguir dando la espalda a los aspectos más vulnerables de esta tierra

esta convivencia entre protección de actividades agroganaderas es lo único que se ha mantenido inmóvil

en todas las mociones todas las proposiciones creo que aquí ha habido como cuatro o cinco

y siempre se ha mantenido de hablar los usos y costumbres es lo único o sea los firmantes han podido cambiar las posiciones han cambiado pero

y el seguir permitiendo y el seguir manteniendo la actividad agrícola y ganadera se ha mantenido hoy aquí se va a votar con todo lo acordado desde el dos mil nueve una vez más el gobierno vasco

y lo que pretenden es también dar carpetazo al asunto como bien has dicho parece que los ecosistemas y la biodiversidad en euskadi están en venta ni los montes de vitoria ni el lobo ni el en china lo primero son los pozos de gas los parques eólicos

siempre hay una excusa para explotar a la naturaleza hay que evolucionar adaptarse a los nuevos tiempos hace falta una visión más biocentrista de la naturaleza su riqueza en sí misma
y que debemos proteger y preservar pues en este parlamento la naturaleza siempre pierde eskerrik asko angulo jauna

ni lo son urkiola gorbea izki valderejo

los cinco parques naturales de araba entre los dos entre el señor alonso y el señor suso yo creo que lo que nos han hecho básicamente es una constatación

el reconocimiento de ello porque ustedes lo que nos vienen a decir es que pensar una figura de protección como un parque natural mal porque al final esto complica la vida de la gente la vida de

en el entorno y claro que en este caso

oposición social esa a la tanto problema tenemos para escuchar en algunos casos

sí que nos parece importante en vez de ver cómo podemos pulir diferencias y sin embargo nos vamos a decir a denostar la propia figura del parque natural pues tienen otros cinco

porque lo interesante de nombrar a vitoria parque natural existía en origen en dos mil cinco existía en el dos mil doce cuando se abrió el porn y sigue existiendo hoy

hay cincuenta y uno especies del catálogo de especies protegidas hay quince paisajes sobresalientes hay catorce especies

de especial interés y no todas están en los montes altos de vitoria no

y cinco prioritarios no todos están en los montes altos de vitoria pero claro no hay que mezclar debates verdad es decir

tenemos que estar pensando en los valores naturales que puede tener para defender

eso sí si los concejos nos ponen pegas

pero si resulta que décimos que hay otro tipo de intereses como el gas o los que sean que no me quiero centrar en eso

ahí no hay que mezclar debates no claro el de los concejos sí

el de todo otro tipo de cuestiones que están encima o alrededor del parque natural de los montes de vitoria gasteiz eso sí eso son debates que no

que importan y debates que hay que dar porque claro en la aprobación inicial se decía por ejemplo que

habitantes que además tiene unas zonas que son muy potentes para hacer

de infraestructuras o lo que sea y claro cerrar la puerta a eso es complicado a pesar

no sé dónde lo ha anunciado entiendo que alonso lo anuncia hoy aquí en contra

cuando se decía en el documento de aprobación inicial se estima que la figura de protección que más al mismo es la de parque natural elena moreno viceconsejera la legislatura pasada también estimaba lo mismo

y ahora de repente ustedes dicen no no no hemos descartado los socialistas hemos descartado vale muy bien allá cada cual con lo que hace pero desde luego para mí representar una noticia lo que

es por lo que estoy viendo hacia lo que van a ir es hacia que este proceso quede cerrado no sé si en falso pero bueno

de la que merece el conjunto de lo que se ha propuesto como parque

de vitoria y lo que van a conseguir es que sigamos teniendo un espacio desordenado un espacio en el que los habitantes de gasteiz salen

y en vez de tener un sitio regulado en el que se sabe dónde se tienen que aparcar en el que se sabe cuáles son los senderos y las rutas a seguir pues sin más seguiremos yendo cualquier día por ahí nos encontraremos con

a cualquier época del año haciendo lo que le da la gana por todos los caminos

molestando a los habitantes de los concejos como cuando se ha abierto la posibilidad de moverse por ahí y eso sí seguiremos manteniendo abierta todo tipo de posibilidades de oportunidad que da el hecho de no tener aprobado el parque nombrado digamos yo

por qué lo llaman amor a los concejos

no sé si es que cumplo con el canon del guipuzcoano profundo pero no acabo de entender la pregunta y ese vínculo entre el amor y el sexo si quiere luego en un café me lo explica y lo debatiremos tranquilamente

vamos a ver y puesto que tampoco quiero intervenir en el siguiente punto no me pienso alargar en absoluto ya se lo adelanto porque creo que debatir dos veces lo mismo tampoco viene a ningún lado sí que me gustaría hacer una especie de reflexión final y unirla por cierto si se me permite

en el anterior punto ahora venimos con el acuerdo de parís se ha vuelto a citar aquí yo creo que es uno de los acuerdos

nos ha interesado para una cosa o para la contraria resulta ser que hay que descarbonizar pero

cuidado que no hay que tomar una serie de decisiones pero hay que intentar no molestar entonces yo creo que sinceramente es momento de centrar un poco el tiro

de sindicalista donde nos tocó tomar un acuerdo un acuerdo duro un acuerdo que realmente implicaba e implicaba a toda una plantilla cuando lo terminamos de firmar en la primera reunión en la que nos reunimos para decidir cómo íbamos a aplicar ese acuerdo que habíamos firmado

pidió la palabra y dijo bueno ya tenemos el acuerdo ahora yo propongo que no se aplique en los próximos dos años ante la sorpresa de todos los allí presentes nos explicó es que ya hemos llegado al acuerdo pero es que si ahora lo aplicamos se va a cabrear la gente

entre gobernar y estar en la oposición siempre hay que tomar decisiones y siempre hay que asumir que ciertas decisiones

es buscar la mejor decisión posible que concilie los intereses de todos los agentes implicados y sirva esta réplica mía para el punto uno para el punto

cinco que será el que volvamos a debatir y en el que no quiero volver a extenderme

sigo pensando lo mismo sigo pensando que una cuestión es proteger la biodiversidad

y otra cuestión totalmente diferente puede ser como fue en su día en este debate

cada cual es un debate totalmente diferente que confluyen pero hay que tratarlos desde formas diferentes ya lo he dicho aquí y lo vuelvo a decir si lo que tenemos es un problema por el pozo armentia y todo lo que ello conlleva

ese es el camino si lo que queremos es proteger la biodiversidad busquemos cuál es la fórmula más interesante

que concilie los intereses de todos los agentes implicados porque los concejos más allá de una cuestión folclórica son instituciones que tienen sus propias competencias y que también hay que respetar que también hay que respetar

presidente andrea bueno señor otero a la pregunta conteste usted mejor porque es

los grupos cuando en ese sentido sabe qué pretenden o qué no pretenden no somos nosotros los expertos en esa materia por tanto

bien mire yo llegué a la diputación en el año noventa y uno director de agricultura se declaró el parque natural el primero de todos urkiola no tenía ni plan de ordenación en aquel momento

allí empezó a desarrollar todo aquello y al final nada más llegar a diputación pues también

los presupuestos y los trabajos a llevar a cabo para ello para aquellas zonas que estaba prácticamente ya desértica impulsarla

trabajamos en la declaración de parque natural de gorbeia le puedo decir que si usted va la limitación verá mi nombre todavía por allí también el del señor tellería en lo que verá que menos guapo nos ponen cualquier cosa

trabajar en la declaración de un parque natural y ya por último la segunda legislatura como diputado se declaró el parque natural de izki el parque natural de izki

de parques naturales sé algo de negociación también en ese sentido

yo también le puedo demostrar mi trabajo en esta materia amplios y de mucho tiempo en ese sentido

en aquellos años se aprobó la ley de conservación de la naturaleza en el año noventa y cuatro si no recuerdo mal señor tellería y allí las figuras que se iban a proteger se llamaban biotopos se llamaban árboles singulares se llamaban parques naturales pero luego

en el dos mil y allí la unión europea cambió las nomenclaturas y

y esas zonas en principio están dentro de un contexto comunitario y protegen o tienen digamos condiciones de protección mayores que las que puede tener un parque natural

digamos otro nombre puede ser otra cosa pero el año dos mil se cambia la política de conservación en europa

desde ese momento en álava el terreno que más conozco

hasta un veintisiete por ciento de la del territorio que es lo que tenemos en zonas conservadas

que no se ha dedicado a conservar la naturaleza todo lo contrario un veintisiete por ciento como le digo en ese sentido por tanto creo que en este momento de discutir entre zonas zep y parques naturales no tiene ningún sentido porque la figura de protección pueden ser las mismas en cuanto a los fines que se puedan conseguir pero por otro lado usted decía quá va a pasar van a ir con los quads podemos encontrarnos a cualquiera por esas zonas

montes de vitoria o en la que puede ser de parque se aplican entre otras la ley de aguas

del marco del agua la ley tres barra noventa y ocho de protección del medio ambiente del país vasco de ordenación de márgenes de los ríos y arroyos de la cav la norma foral de montes que regula los montes roturos y la ley de conservación de la naturaleza del país vasco

el catálogo de los montes de utilidad pública la norma foral que regula el uso y conservación de caminos rurales el plan general de ordenación urbana de vitoria que como saben se aplica también

ocho barra dos mil cuatro que regula los cotos de caza la propia ley de caza que aprobó este parlamento dos barra dos mil once la norma foral uno barra dos mil doce de itinerarios verde

declarada de montes de vitoria y la a usted le parece que seguro que hay muchas más

poca normativa para poder aplicar para poder evitar esas cosas que usted dice que pueden pasar tenemos normativa suficiente para poderlas aplicar y para que se mantenga la calidad y la conservación de los montes de vitoria digamos de la parte de

gracias señores parlamentarios como decíamos a primera hora de la mañana hoy el protagonismo lo tiene el medio ambiente y la biodiversidad y lo tiene también álava ya hemos recordado todos la génesis del plan territorial sectorial de energía eólica

y la capacidad que tuvo para concitar un amplio rechazo social el rechazo de la práctica totalidad de las fuerzas políticas el rechazo de las tres juntas generales y también por unanimidad

exigiendo su paralización y la elaboración de un nuevo plan es la posición que siempre mantuvimos

porque creemos que es la posición responsable de quienes defendemos el medio ambiente

y el desarrollo de las energías renovables fue también la posición que defendimos

en relación con la estrategia vasca de cambio climático necesitamos un plan vasco de energías renovables

de energía renovable en el horizonte dos mil cincuenta es un objetivo todavía lejano en la práctica y en el tiempo como he dicho esta mañana

de cualquier modo y a cualquier precio o con cualquier coste ambiental pero nos encontramos

con que el gobierno vasco que ha cambiado de posición y ahora le vale cualquier ubicación con cualquier impacto y sin disimular siquiera

lo digo porque cuando parecía que arrancaba la tramitación del plan de energías renovables después de años de aplazamientos alguien ha decidido anticiparse

con el objetivo de sortear tanto el plan de energías renovables como las exigencias que incorporarán las dos leyes ambientales hoy en tramitación en este parlamento

con impulso de dinero público dinero de todos pretende implantar cuatro parques eólicos en azazeta

no consta que hayan explorado otras áreas u otras alternativas como dice la señora consejera el viento está allí

que les gusta decir a otros con manifiesta simpleza

que está el viento y están más cosas están paisajes excelentemente conservados

o territorios declarados o propuestos como parque natural

que forman parte de red natura dos mil es decir todo aquello que todos hemos acordado preservar

excluyan estas áreas de la búsqueda de emplazamientos por mucho viento que haya hay valores riquezas más importantes incompatibles con el desarrollo industrial lo pidió expresamente el plan mugarri

que previó que estas áreas saliesen de los planes energéticos no hablamos de lugares

el león dormido es toda una referencia social y cultural en la rioja alavesa

alavesa arkamo es uno de los cuatro mejores territorios para el águila real en europa los bosques de azazeta

biodiversidad sorprendente y también en iturrieta

de las laderas sobre las que irían los molinos es aquí también donde con más frecuencia se avista al quebrantahuesos en euskadi ejemplares jóvenes que llegan hasta asturias

la transformación masiva del paisaje el impacto visual irreversible el daño sobre la

de toda discusión el impacto sobre el terreno sobre áreas naturales excelentemente conservadas la erosión causada por los caminos para la maquinaria las grúas o los camiones que deben transportar elementos de decenas de metros de longitud es algo que suele pasar

como reales son las líneas de alta tensión para la evacuación de la energía producida en muchos casos en las mismas zonas en las que existen convenios y protocolos para corregir las líneas de alta tensión

residentes o migratorias alguien debería leer despacio la recomendación general del ararteko sobre aves e instalaciones eléctricas del pasado ocho de febrero hace menos de mes y medio porque el impacto

eólico supera con creces el de cualquier tendido alcanzar objetivos en la gestión política es una cosa hacerlo de cualquier manera otra bien distinta nadie plantea transformar el palacio de la diputación foral el parque de la florida o la torre de iberdrola en viviendas sociales

pues bien con la mentalidad de quienes impulsan estos parques eólicos esos lugares serían aptos para tomar tales iniciativas el terreno o el edificio están ahí hagámoslo el viento está ahí intentémoslo y para ello en falsear la estrategia vasca de cambio climático una cosa es el origen

y otra muy distinta que deba producirse en el país vasco un territorio pequeño densamente industrializado y humanizado

bien conservados deben tener prioridad frente a las instalaciones energéticas frente a la industrialización de los mismos lugares que décimos que queremos preservar para las generaciones futuras

responsables del retraso del plan de energías renovables son quienes hoy

gobierno no hay razones para las prisas si la hay para trabajar en los consensos para preservar los lugares insustituibles asombrosa carrera por alterarlos precisamente cuando más de manifiesto están los valores que atesoran hay que preguntarse lo hacíamos esta mañana

sacrificado es el patrimonio natural de los alaveses de todos los vascos quién se beneficia a quién favorece ensuciar

de sostenible la actuación de un gobierno o una multinacional prestigiosa cuando adopta esas decisiones a quién puede prestigiar este desatino a cambio de qué confluyen los intereses del eve

no faltan porque no consta que haya otras ubicaciones en exploración no las hay o simplemente son menos productivas el criterio es el viento o la intensidad de la rentabilidad solo hay viento en álava solo en espacios naturales solo donde las juntas generales dijeron que no se tocara a mí

de álava y del país vasco nos contarán que la decisión es de otros del ministerio

sigue siendo mucha casualidad por eso en vez de empezar arrasando lo más valioso de nuestro territorio queremos empezar recuperando los consensos en torno al plan de energías renovables en torno a las leyes de patrimonio natural y de administración ambiental que tenemos en trámite en torno

de generación de energía esto no puede ser una carrera de listos para sortear la planificación y la legalidad menos todavía puede el gobierno vasco el eve participar en esa carrera que es una carrera contra el interés general y contra este parlamento

meses por ello pedimos el respaldo de la cámara para nuestra proposición de ley transada

ni mientras se elabora ni en su aplicación los más valiosos elementos de nuestro paisaje y nuestra biodiversidad

de evitar un desatino contra los alaveses contra el patrimonio natural de todos los vascos y contra el interés general gracias eskerrik asko larrea

hemos expresado en cualquier caso bueno pues bienvenida sea la oportunidad para volver a incidir en ciertas cuestiones que nos parecen importantes

que no se puede por un lado afirmar que hay que ir

y a su vez decir que esto no sería posible hacerlo en un plazo acelerado si no entramos de lleno en espacios protegidos creemos que es falso y creemos que también es bastante

ir hacia una transición energética que hubiese respetado o que respetase en el medio plazo espacios protegidos

suelo rural creemos que el único interés por el que

estos proyectos o se están centrando estos megaproyectos en araba tienen que ver con que es más barato con el uso del suelo en araba a diferencia de bizkaia y de gipuzkoa y a su vez también

acuerdos y con la capacidad de nicho de negocio que ofrece a determinadas empresas con las que se están alcanzando los acuerdos de colaboración y los convenios

las mismas empresas no creemos que desde luego el elemento de la intensidad del aire sea el criterio que realmente esté rigiendo

además es que nos parece bastante preocupante el sprint que ha lanzado el gobierno vasco para ya digo favorecer a determinadas empresas antes de la aprobación del pts

y también de ciertas leyes en tramitación tanto en el ámbito estatal como aquí a nivel autonómico creemos que la voluntad de hacerlo tan rápido teniendo en cuenta además que se decía que los pts hay previsión de tenerlos

que se tiene respecto a acelerar los plazos para esto no tiene ningún objetivo más allá de favorecer a determinadas empresas y no verse limitado por ya digo las limitaciones que previsiblemente figurarán en

y en estas leyes que se están tramitando en otros en otros ámbitos

modelo de impulso de energías renovables

fomentando la colaboración con pymes y cooperativas energéticas mediante una descentralización de lo que ahora es un monopolio energético creemos que y ya se ha mencionado si el plan mugarri en dos mil dos mil veinte un plan para el desarrollo de las energías renovables en el territorio histórico de álava planteaba o promovía la instalación de minieólicas así además lo decía en su texto literal en polígonos industriales y evitar parques eólicos

cómo es posible que respecto a lo único en estos momentos en vigor ni siquiera respecto a esto haya ninguna consideración

eólicos por qué no ha tenido en cuenta este plan y si no se lo han leído y el pts de energía eólica está suspendido desde dos mil nueve

en base a qué plan están proyectando parques eólicos

a nosotros nos parece que esto es básicamente una barra libre

en euskadi respecto a este tipo de megaproyectos antes de que culminen los plazos así que obviamente o incluso al único plan que podría estar vigente como es el plan mugarri

de la minieólica como afirmaba y ya que estamos construimos uno de los parques en la zona protegida de entzia

nos parece que es una barbaridad tampoco voy a reiterar mucho más los argumentos que esta mañana he expresado creemos que

mercantiles de determinado oligopolio energético que en colaboración con el gobierno vasco pues intenta acelerar el proceso sí de descarbonización de nuestro país

bajo criterios de rentabilidad económica no protegiendo o bajo principios de conservación del espacio protegido en este caso creemos

no debería de ser así creemos que es perfectamente compatible ir a la descarbonización no tener que incurrir en espacios protegidos en euskadi para este tipo de inversiones y tampoco que sea necesario hacerlo siempre con las mismas empresas energéticas

que independientemente que estuviera claro como está siendo que hoy se iba a aplicar el rodillo el grande con los temas que había y como así está siendo

porque tenía la impresión de que aunque perdiéramos votaciones ganábamos debates y

sino porque tengo la sensación de que hay algunos debates en el aspecto energético con la cuestión energética el que ustedes terminan entrando en razón y creo

de que vayan entrando en razón en esto también y estoy pensando también en el fracking durante tantos años apoyado

o la insistencia en separar la transición energética y el cambio climático

o tantos años defendiendo la cuestión de la generación distribuida y ahora nos enorgullece la verdad

hablando de cooperativas energéticas y generación distribuida y tal a eso es a lo que me refería y en la cuestión del respeto a los espacios naturales protegidos

no desisto en que al final vayan entrando en razón niri

creo que ha sido un intento de caricaturizar el lugar en el que estamos más que intentar describir el lugar

desde hace tiempo de responsabilidad en la cuestión energética venimos diciendo que ese es un tema gordo serio que nos va a ocupar los próximos años que esto hay que hacerlo conjuntamente que esto es una cuestión de país que esto no se puede hacer saltándose

como la que estamos debatiendo hoy y sin embargo

estos años últimos años y más ahora está habiendo muchos muchos proyectos energéticos y no nos ve aquí protestando por todo porque todos nos pilla mal lo que pasa que sí que creemos que tiene límites porque usted lo solventa con decir toda actividad tiene impacto y ya está como toda actividad tiene impacto bueno pues el que tenga que tener y ahí

en todo tenemos que poner unos límites en esto también

pero de querer estar y lo ha expresado así me ha parecido grueso el asunto yo creo que de hacérselo mirar

del partido de intentar como trasladar

a los que se están quejando por una brizna de hierba ha sido la expresión concreta hablar de las

como la gente que está preocupada con el tema entre ellos nosotros y nosotras

yo le quería poner cuatro datos encima de la mesa

de lo que está hablando este es el edificio

de euskal herria la torre iberdrola ciento sesenta y cinco metros para referencia vitoriana el skyline de vitoria las torres de salburua tienen setenta metros esto es lo que se va a poner

doscientos metros de altura cada una ciento cincuenta de vuelo

cada pala hacia cada lado o sea estamos hablando de esto eh esto es un poquito más que una brizna de hierba en una zona de especial conservación en una zona de protección de necrófagas

está uno de los dos únicos muladares es decir donde se alimentan las necrófagas de araba a cien metros

digo que estamos hablando de un tema eh y los números son un poquito más que una brizna de hierba

que se van a poner necesita casi seiscientos metros cúbicos de hormigón es decir en total ocho mil novecientos veinticinco metros cúbicos de hormigón en iturrieta solamente es decir

en la novecientos hormigoneras llenas en una zona de especial conservación y más de mil

por pieza es decir más de un millón de kilos de acero en iturrieta otro tanto

dieciseis kilómetros de caminos de entre cinco y seis metros de anchura aparte de la zanja de conexión eléctrica y demás una ocupación permanente

metros cuadrados de espacio de la zona zec todo eso sin contar con lo que luego se ve

es hacerle un flaco favor a su propia posición y me parece

estos proyectos a la evaluación de impacto ambiental

o sea que el propio informe de evaluación de impacto ambiental me está diciendo que no se ha medido y estas son menciones que estaban hechas a cincuenta y cinco metros y esto el book que lo va a tener a ciento veintisiete poco que ver eta bestea suso jauna ez dago no vale tampoco ir a la radio esta semana y simplemente mentir espero que alguien diga eso ha sido un lapsus ha sido un error

no se van a colocar los eólicos en las zonas de especial conservación en la red natura dos mil y leemos los informes de impacto ambiental y en iturrieta y arkamo van los treinta y cuatro las treinta y cuatro máquinas eólicas en

unanimidad dieciocho de junio de dos mil nueve unanimidad el parlamento insta al gobierno a que suspenda la tramitación administrativa de los parques eólicos en curso para permitir durante este periodo de suspensión la consecución de un consenso interinstitucional y social respecto a los planes en marcha e insta a iniciar antes de final de dos mil nueve la elaboración

emendakin originala firmado por un tal joseba egibar artola el diez de junio de dos mil nueve

de paralizar la tramitación administrativa de todos los proyectos eólicos que actualmente están en tramitación hasta

citadas propuestas cuál era la citada propuesta la citada propuesta era remitir al parlamento las conclusiones del estudio referente a la evaluación

de los proyectos eólicos claro que eso en román paladino y con la modificación de la ley de impacto ambiental estatal del dos mil trece se convierte en una evaluación ambiental estratégica es decir tenemos que hacer una evaluación conjunta que decía el señor egibar en el dos mil nueve pasarla a estratégica

en conjunto y a partir de ahí empezar a hacer las cosas ordenadamente que es lo que estamos pidiendo ez dugu

que como soy nuevo en esta cámara no sé este tema me parece más yo creo que el señor otero estaría encantado con el

estar estar y no parar hasta que uno se sienta no yo creo sinceramente creo que el debate

es más hemos llegado incluso a mezclar los textos presentamos como enmienda lo que habíamos presentado como el texto original en el punto uno presentamos

junto con el partido nacionalista vasco presentamos la misma enmienda porque entendemos que estamos constantemente debatiendo sobre lo mismo ha llegado ya un momento en el que me daba la sensación señor otero con todo el aprecio que sabe usted que le tengo que ya creía que estábamos haciendo comentario de textos

bueno yo creo que por lo menos en lo que a mí respecta le debemos un respeto

discutiendo sobre la misma materia he bajado simplemente porque como soy un firme defensor de la cortesía parlamentaria no quería que nadie pensara que de alguna forma no estaba atendiendo con el debido respeto y con el debido interés un tema que se trae a este pleno

todas las posiciones considero que ya han sido expuestas e incluso muchas de ellas votadas

legebiltzarburu andrea egun on guztioi berriz ere no sé si empezar con el académico decíamos ayer o con el radiofónico gol gol gol o para los fans de iragorri bacalao bacalao bacalao porque el gol que les han metido hoy a los integrantes de esta mesa

dos veces sobre el mismo tema que la misma discusión se duplique

tiene su aquel ya he discutido con usted en la primera tanda señor otero ahora no pretendía pero en fin en primer lugar le tengo que decir aquí el que no se consuela es porque no quiere pero tiene una

histórico que nos ha hecho eso por un lado por otro en fin ya lo debatiremos en otra ocasión pero que usted coja una digamos una expresión concreta para de ahí pasar a dar una clase magistral bueno pues se lo acepto pero en cualquier caso yo no pretendía

sobre todo avisar avisar y avisarles a ustedes básicamente que les suele gustar hablar de la licencia social

ustedes y nosotros que nos dan los ayuntamientos que nos dan las diputaciones contra lo que yo quería avisar es

velada amenaza de cuidado porque si las cosas no van por donde yo quiero en base al peso específico que yo tengo en los diferentes ámbitos institucionales ahí tienen ustedes la licencia social o la respuesta social

los que somos más vitorianos que tomás acebal nos conocemos todos y resulta

o de una organización unipersonal

o de ciertas personas que según el día de la semana que toque pertenecen a una u otra repartidora de licencias sociales y eso sí cada dos tres o cuatro años en sus listas electorales en la primera fila de sus mítines por eso esa es contra la licencia social que yo avisaba no coja el rábano por las hojas por lo que le he dicho de la brizna de hierba porque ahí también

le ha faltado la última parte del artículo uno cuando se dice

la aplicación de la normativa ambiental aprobada durante los últimos años en torno a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de los diferentes parques eólicos que actualmente están en tramitación

de la red natura dos mil y con ese objetivo nos vamos a quedar no voy a entrar al resto de cuestiones que usted sí ha entrado porque

ni siquiera estamos de acuerdo con el toque liberal que le han metido desde elkarrekin podemos porque

bien si se puede abrir lo primero que pasa cuando

es que el gobierno perdería su parte de cuota y lo segundo ya sé que ustedes tienen sus obsesiones les gusta hablar de los oligopolios pero probablemente a una licitación de este tipo pues supermercados loli de villabuena no acudirán verdad

señora larrea aquí venimos a debatir a discutir y si se puede y se quiere después a acordar de manera más sosegada o más vehemente pero a debatir y no a insultar y es que tiene usted la mala costumbre de utilizar palabras demasiado gruesas que en lugar de enriquecer el debate

hoy hablaba de prevaricación por no hablar de otras cosas que ha mencionado y a mí mire me parece mentira que con la experiencia adquirida en su partido aun no sepa que los delitos se denuncian y se dirimen en los juzgados y en los tribunales

no juguemos con fuego recuperemos la política su buen nombre hagamos las cosas con nivel por favor en cualquier caso se empeña usted en hablar de dos mil dos de dos mil nueve de planes caducos

pero estamos en dos mil veintiuno y desde entonces han cambiado muchas cosas muchas por ejemplo entonces no teníamos como he dicho antes el marco legal ambiental necesario

teníamos los planes de gestión de estas zonas porque ustedes en su mandato en la diputación no los desarrollaron y tuvimos que

desarrollando la estrategia klima araba dos mil cincuenta

en el desarrollo de las energías renovables poco más que añadir volviendo al símil futbolístico de hoy señor otero empatan ustedes a cero

cero el combinado supuestamente centrista cero el gobierno vasco

naturales con proyectos insostenibles es algo

en todo el mundo es que voy a decir que es que ni siquiera trump consiguió salirse con la suya

hay parques que no suscitaron ningún tipo de conflicto el puerto de bilbao

no tiene no hay ningún problema con que se haga ese tipo

quizás es que haya que instalar parques más reducidos haya que hacer un estudio

de energías renovables para no utilizar el del año dos mil dos así de claro es que en realidad no estamos en contra de las energías renovables estamos en contra de unos emplazamientos que nos da la sensación que nos quieren meter

unos parques eólicos en unos lugares donde se debe preservar la sostenibilidad el medio ambiente no hay más es que tampoco le voy a dar más vueltas porque ya hemos debatido a primera hora sobre este tema

preservar zonas de alto nivel de protección eskerrik asko larrea andrea